eusko jaurlaritzak se trata de un ejercicio que conjuga la acción del gobierno vasco con los objetivos de desarrollo sostenible definiendo metas compromisos e indicadores el pasado año el gobierno vasco participó por primera vez en el high level political forum organizado por naciones unidas en nueva york

sin estado de todo el mundo se trata de un punto de encuentro en el que gobiernos de diferentes países organizaciones internacionales personas expertas

el gobierno vasco ha sido nuevamente invitado a dicho foro y según hemos podido saber el lehendakari participará en el mismo para presentar el modelo vasco y el grado de avance en los diecisiete

por tener un lehendakari que aprovecha todas las oportunidades que se presentan para llevar la voz y la experiencia de euskadi a foros de gran repercusión que nos den a conocer en el mundo

en asumir el compromiso con los diecisiete objetivos de desarrollo sostenible la valoración continúa forma parte del modelo de buen gobierno

hemos incorporado un panel de cincuenta indicadores relacionados con los objetivos de desarrollo sostenible el mes de marzo presentamos en este parlamento el informe

el grado de avance es destacable en reducción de la tasa de pobreza disminución de emisiones de gases de efecto invernadero generación de oportunidades de empleo reducción de la tasa de abandono escolar avance en la igualdad de mujeres y hombre

aprobaremos un nuevo informe del grado de cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible que será remitido también a esta cámara esta experiencia pionera ha atraído la atención de naciones unidas como usted señora berriozabal ha dicho en julio del año dos mil dieciocho euskadi participó por primera vez en el highl level political forum la conferencia organizada por naciones unidas en nueva york

euskadi ha vuelto a ser convocada y este mes de julio próximo tendré la oportunidad de presentar en naciones unidas el modelo vasco de desarrollo humano sostenible destacando nuestro compromiso y contribución a cuatro retos de carácter global

crecimiento inteligente y oportunidades de empleo para la juventud y cohesión social y atención a las personas más necesitadas

avanzar en una euskadi mejor y también en un mundo más igualitario y solidario nazio batuen high level political forumean parte hartzea

para dar a conocer la realidad de euskadi basque country en el mundo vamos a presentar

sin estado avanzada solidaria y abierta que defiende los principios de subsidiaridad y gobernanza multinivel que aspira a ganar su propio espacio

vamos a defender por lo tanto el autogobierno reconocido como un legado irrenunciable vamos a trabajar con el objetivo de ampliar los acuerdos para alcanzar un nuevo estatus adaptado al contexto actual en el estado y en europa que responda

este es un pueblo que avanza paso a paso tenemos la oportunidad de alcanzar un acuerdo amplio que respete nuestra singularidad

y habilite una relación de bilateralidad efectiva con garantías en el marco de un estado plurinacional el concierto político

logrados la dimensión y la relevancia de su objetivo creo que merece el tiempo que han demandado para tratar de forjar el consenso más amplio posible

propuestas que nos pudieran conducir a un fracaso en este sentido y en este último pleno de este periodo de sesiones

pero hemos de ir en medio de la fraternidad de la unión de pensamiento y de corazón

nuestro lado unas veces a cargo de las derechas monárquicas otras a cargo de las izquierdas extremas esto es lo que decía el lehendakari agirre aurrera egiteko gure eredua elkarrizketa

etapa que inicia agradezco su contribución y su decisión de mantener el compromiso político con este país ahora desde una nueva posición eskerrik asko

para el verano de cara a preparar el próximo periodo de sesiones en el que se abordarán

no nos vamos a pronunciar en este caso sobre unos presupuestos por ejemplo hasta que no veamos si las medidas que el gobierno propone trata las brechas los desequilibrios y los retos que definen

o si es un tratamiento que va a la raíz del problema y que tenga como objetivo transformar

direnak por ejemplo ante la sangría que supone la violencia machista nosotros proponemos medidas que extirpen el machismo de la sociedad

ante la emergencia climática podemos dar grandes titulares o ser valientes y proponer medidas que cambien nuestra economía

de desigualdad de brecha salarial de desequilibrios territoriales contaminación precariedad nuestra apuesta es

ni paliativa y buscar métodos para solucionarlo son los deberes que nos llevamos

es responsable ante el resto de la sociedad en las actuales circunstancias de emergencia climática de posible desaceleración económica

y desigualdad social y de género seguir apostando por el mismo modelo pero con tiritas desde luego sería una gran irresponsabilidad y asegurar que eso es suficiente

le digo que a la vuelta del verano examinaremos sus presupuestos bajo la lupa transformadora

van a traer aspirinas o van a traer tratamientos de choque yo esta es la tarea que le pongo a su gobierno para este verano aprender a ser valiente

señor martínez esto de aprender a ser valiente asumiendo la responsabilidad de un gobierno de minoría

las conoce bien porque todas ellas están sobre su mesa señor martínez

los periodos de sesiones del parlamento el gobierno tiene marcada una estrategia programa de gobierno y plan de gestión del que damos cuenta con absoluta transparencia además

planteamos los objetivos con la voluntad de alcanzar acuerdos y favorecer la colaboración las directrices presupuestarias son el ejemplo más reciente

marco económico determinado y destacando objetivos fundamentales para estos próximos meses lucha contra la brecha salarial que usted ha mencionado para seguir

mejora de los servicios públicos para seguir siendo la comunidad que mayor cobertura social ofrece a la ciudadanía ayer inició

garantizar la calidad de vida de miles de familias en dificultades y mejorar la lucha contra los casos de fraude que se puedan producir

otra de las cuestiones los fondos de apoyo a las empresas para aportar nuestro grano de arena a mejorar la competitividad a aprovechar las oportunidades de la transformación energético ecológica impulsar la innovación o

y generar más empleo de más calidad son retos fundamentales para el país en los que podemos avanzar más si su grupo quiere aportar su grano de arena

la utopía realizable podemos soñar si permanecemos despiertos señor martínez todavía nos queda cerrar junio y todo julio por delante
espero que isiltasuna mesedez tras el mes de agosto todas y todos vengamos con los trabajos hechos

avanzando en mejorar la calidad de vida y bienestar de las personas esta es la voluntad diaria del gobierno la herramienta de los presupuestos es fundamental
y la puerta para aportar por parte del gobierno está abierta eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna mesedez isiltasuna

sí gracias presidenta señora consejera esta semana el departamento de trabajo y justicia y más concretamente el organismo autónomo osalan ha sido noticia por dos hechos
como no podía ser menos relacionados con la seguridad y salud en el trabajo y la prevención de riesgos laborales entre los días veinticuatro y veinticinco lunes y martes de esta semana

este congreso se organiza anualmente por la organización iberoamericana de seguridad

este año el gobierno vasco el departamento de trabajo y justicia y el instituto vasco de seguridad y salud laborales osalan les felicito porque ha sido un evento de amplia participación de países iberoamericanos

u otros altos responsables institucionales hacer posible que este congreso se haya celebrado en euskadi me parece que es un reconocimiento a la labor que desempeña su departamento y osalan en pro a la seguridad y salud laborales lograr que un acto de tal envergadura como este se celebre en nuestra tierra es muestra de nuestro prestigio en el orden mundial en esta materia se ha trabajado tanto en plenarios como en grupos especializados que han desarrollado temas de candente actualidad

su alineación con los objetivos de desarrollo sostenible los riesgos emergentes el diálogo social en la materia o el impacto de la digitalización y las nuevas formas de trabajo

la otra noticia no se desvía para nada de este contexto ustedes han anunciado la tercera campaña de sensibilización sobre la importancia de seguridad y salud en el trabajo

ha aportado a la sociedad datos sobre siniestralidad procurando que los datos sirvan

este problema de la siniestralidad y por otro para desechar la idea de que los accidentes de trabajo son inherentes con él señora consejera ha presentado usted esta campaña como medio para involucrar a toda la sociedad a los trabajadores trabajadoras y a las empresas en la actividad preventiva

es la tercera campaña que ustedes acometen tres años de legislatura tres campañas de sensibilización junto a una labor diaria de control e investigación

hacer coincidir el lanzamiento de la campaña con el veintiocho de abril el día mundial de la seguridad y salud

por razones obvias como era la coincidencia con la campaña electoral y la celebración de las elecciones han optado por retrasar esta presentación y hacerla coincidir

lo cual nos parece también un acierto por lo tanto señora consejera

osalan para el desarrollo de la campaña anunciada muchas gracias y quisiera

hoy también es el último pleno de nuestra compañera rafi romero que nos deja para irse a la diputación foral de gipuzkoa quiero despedirme hoy aquí y

de ella ha sido un placer tenerla en esta legislatura con nosotros y por supuesto te deseamos todo lo mejor en

eskerrik asko presidente andrea lehendakari sailburuok legebiltzarkideok egun on guztioi señora sánchez efectivamente la importante labor que dentro de su quehacer diario

la participación activa de los agentes sociales para avanzar en la prevención de riesgos laborales y en la seguridad y en la salud

por otra parte es imprescindible que los empresarios sean proactivos e incorporen a la gestión normal de sus empresas la prevención pero en el departamento de trabajo y justicia y en osalan estamos empeñados en que la cultura de la prevención implique a toda la sociedad por eso elegimos este tipo de campañas periódicas para trasladar a la ciudadanía un concepto esencial para nosotros como es que un trabajo de calidad

a la normalización e incorporación natural de las conductas seguras y saludables en el trabajo

como elemento para mejorar en eficiencia y productividad en esta tercera campaña nos vamos a centrar en desarrollar el concepto esencial que la enumeraba antes es necesario incluir

como requisito imprescindible para poder considerar el trabajo como un trabajo de calidad como un trabajo digno no hay trabajo digno no hay calidad

la conciliación la igualdad y la integración social pero si no se vela por la seguridad y la salud de las personas trabajadoras no será en un sentido pleno un trabajo digno

que en este año celebra su centenario y está comprometida en promover el trabajo seguro saludable y digno y está trabajando por incorporar la seguridad y salud laborales

insisten en estas ideas nos proponemos consolidar el compromiso de las personas empresarias y trabajadoras con la seguridad y salud en el trabajo concienciar

la seguridad y salud en el trabajo entre los indicadores y valores imprescindibles para poder considerar un trabajo como digno plantear el mensaje desde una perspectiva inclusiva

y afianzar el mensaje de que la seguridad y salud en el trabajo es una cuestión relevante que incumbe a toda la sociedad

la seguridad y la salud son la base de un trabajo digno segurtasuna eta osasuna dira lan duin baten oinarriak dira como pueden ver en el cartel que les muestro la imagen central escogida para la campaña es un iceberg que sobresale

imagen con la que se pretende transmitir que la seguridad y salud laborales

y aunque no se vean son imprescindibles para que todos los demás requisitos de un trabajo digno se puedan implementar la difusión de esta imagen a través de diversos medios y soportes

en las redes sociales espero que esta campaña sea un éxito y por nuestra parte vamos a seguir trabajando todos los días por que en euskadi mejoremos en seguridad y salud laborales y por imbuir a toda la sociedad de la cultura de la prevención de riesgos laborales eskerrik asko

señor lehendakari señores miembros del gobierno señorías muy buenos días a todos anda aquí la gente despidiéndose como si se fueran de vacaciones

los miembros del gobierno al menos no se van de vacaciones le diré que nosotros tampoco nos vamos a ir de vacaciones

entre otras cosas porque tenemos casi todo por hacer y

si eso le autorizamos unos días en agosto pero aún no estamos para vacaciones porque hay cosas

y yo le pregunto hoy por una noticia que no es positiva para el país vasco y que no nos deja en buen lugar y que hemos conocido hace poco que es el informe sobre innovación regional que ha presentado la comisión europea en los power point del gobierno ustedes siempre quedan muy bien

pero cuando nos examinan desde fuera pues a veces no obtenemos los resultados que queremos nos pasó en educación nos pasa ahora en innovación que hemos perdido ahora estamos de doscientos treinta y ocho regiones en el puesto ciento treinta y dos

y luego pues hay otros que están peor que nosotros claro el problema es que hemos bajado

respecto a la posición que teníamos en el año diecisiete y que nuestra calificación

pues se habla bien del esfuerzo que hacen las empresas y la inversión privada y no se habla tan bien del esfuerzo que está haciendo el gobierno en esta materia y yo le pregunto qué ha pasado

no se ejecutan los presupuestos que ustedes disponen para las ayudas a las empresas pueden disponer hasta de ciento cincuenta millónes

hemos visto datos de ejecución de la tercera parte apenas cincuenta millónes no hay ideas

le agradezco que algunos días en el mes de agosto nos permita tomarnos

pero que seguirán también siendo productivos a la hora de plantear nuevas cuestiones en todo caso por enfocar bien lo que es la cuestión por la que usted me pregunta

y el informe sirve para reforzar decisiones de mejora que venimos adoptando y para reafirmar el objetivo de que euskadi sea región europea de alta innovación

y pretendo enfocar bien lo que es el propio informe primera la apuesta vasca por la innovación es innegable este informe sitúa a euskadi

lo refleja el propio informe segunda es cierto que en términos comparativos hemos perdido posiciones respecto a otras regiones europeas hemos avanzado pero otros han avanzado más rápido tercera y en este sentido nuestra posición relativa

todas las regiones del estado español todas sin excepción son penalizadas con una corrección a la baja

sin este factor corrector nos mantendríamos como región europea de alta innovación cuarta y más importante este informe utiliza diecisiete variables

en términos de investigación y desarrollo formación universitaria personal de alta cualificación facturación de nuevos productos

nuestra debilidad se concentra en las variables de dos ámbitos innovación en pequeñas y medianas empresas

del gobierno solamente sino que hablamos del esfuerzo conjunto innovación en pequeñas y medianas empresas reconocido en la propia asamblea de innobasque

europa no considera inversión pública las aportaciones del gobierno a los centros tecnológicos eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna

gracias señora presidenta señor lehendakari como yo tengo cuatro hijos en edad escolar

ha suspendido todo el mundo nos han bajado la nota a todos el examen era muy difícil claro luego la culpa es de todos los demás la culpa es de españa

pues ya sé que estábamos mejor que el resto de las regiones españolas es nuestra obligación es el puesto en el que estábamos y cuando empeoramos

reflexionar y dice usted que se lo toma como un acicate

de una sola punta de hierro o sea está usted espoleado pinchado picado acicatado

para el nuevo periodo de sesiones ahora en este tiempo que vamos a aprovechar para trabajar más que nunca bajo la ola de calor

de las reformas que está pendientes son importantes

sus portavoces dedicaron el día a hacer guiños a los de bildu ayer parece que hicimos algo porque aprobamos un par de leyes las aprobó con el partido popular

el acicate es el del partido popular si quiere usted leyes tiene que negociar con el partido popular si quiere usted presupuestos el acicate también es el del partido popular porque somos serios

el compromiso de bajar el irpf si quiere definir qué somos en euskadi

que la ponencia tendrá que fijar posición yo le digo una cosa con sinceridad tenemos muchas cosas que hacer y en septiembre

señor alonso usted sabrá si disolver le conviene mire no haga chistes no haga gracia señor alonso

otras naciones sin estado dentro del estado porque es usted quien me ha dado pie a hacer esta referencia en su primera intervención señor alonso usted me ha dado pie a hacerlo y gracias porque usted constata que somos la región más avanzada

en todo caso vamos a seguir mejorando y esta misma semana el consejo vasco de ciencia tecnología e innovación ha decidido impulsar las iniciativas que nos permitan recuperar posiciones en los puntos débiles que he mencionado he contextualizado en sus justos términos los resultados del informe

no del gobierno solamente reto de país donde es necesario

sumemos todos rememos es necesaria

programas de innovación en pequeñas y medianas empresas como tkgune innobideak o hazinnova

y no nos conformamos señor alonso mantenemos el compromiso con la innovación y la muestra se va a reflejar en los presupuestos del año dos mil veinte qué es esto de que le permitimos será que

la innovación requiere de la cooperación de todos los agentes por eso hay una pregunta que nos tenemos que hacer somos un país innovador más allá

de las empresas de todo lo que nos ha medido este informe es el suyo señor urkullu un gobierno innovador nuestro país

pero lo hacemos con estructuras con herramientas tradicionales las estrategias de país que tenemos

a veces inconexos y eso todavía resulta más evidente cuando en su gobierno el reparto de carteras muchas veces nos encontramos aquí con que son visiones casi de silo una parte lo lleva uno y otra parte lo lleva otro

esta administración nos preguntamos también cuándo va a abordar los mismos retos que plantean las empresas podemos ser un país

con una administración que a veces se dice que es cero punto cuatro cuándo vamos a abordar que la administración pública también absorba la gestión inteligente de los datos

estamos en un entorno competitivo mundial cambiante con aparición de nuevos jugadores que cambian las reglas de juego con cambios disruptivos y eso está pasando en sectores como el de la automoción por ejemplo

los grupos que sustentan al gobierno no lo quisieron apoyar la mayor parte de las iniciativas que traemos a este parlamento

textos que dicen seguir trabajando ante cambios disruptivos proponen seguir haciendo lo mismo

y asumir riesgos y cambios necesarios gizarte berritzaile izateko aldaketa globala

innovar no es sinónimo de usar tecnologías es un cambio cultural que encuentra su primer obstáculo en la propia política sobre todo cuando no hay recompensas

debemos revalorizar la innovación y despenalizar el error esa también es una vieja reivindicación de la red vasca de ciencia y tecnología y hablo desde el hasta los y pasando por el sistema universitario tenemos que poder equivocarnos para poder innovar

fijado para dos mil veinte y habrá que innovar para alcanzarlo finlandia ha sido referente en este

la innovación es toda una cultura del país y su responsable dijo el único experimento fallido es aquel del cual no se aprende nada uste dut horregatik ere

ez nahikoa nos encontramos por tanto en un estudio que confirma que a día de hoy euskadi es más innovadora que hace diez años eso es así ha mejorado

parar en esa mejora ahora bien otras regiones europeas han innovado más han ido más rápido han llegado a un diecisiete por ciento por tanto nuestra posición relativa ha empeorado es cierto

la preocupación y por eso explicamos cuál era la situación de ese informe que es un tanto complicado y lo quisimos explicar pero no porque nos

son estudios complicados y son análisis que hay que hacerlos de una forma yo creo exhaustiva para no solamente explicar el resultado sino para adoptar las medidas adecuadas ese informe me decía usted estaba basado en diecisiete medidas

arrisku izugarri bat eta hori subentzionatu egin behar da pero al mismo tiempo me extraña señora larrion porque en muchas ocasiones personas de su grupo

y que han sido un fracaso pero es que el fracaso en investigación es aprender muchas veces en esta tribuna hagan ustedes repaso de la hemeroteca muchas veces pero estoy de acuerdo con lo que ha dicho usted

hay que subvencionarlo por tanto en eso estamos luego vamos a volver

esa debilidad la parte privada es donde tenemos más dificultades

la inversión privada está bajando del dos mil dieciséis hacia adelante empieza a subir un poco

evidentemente esperamos que los siguientes empiecen a recuperarse pero no es suficiente el ritmo de recuperación del tejido productivo y hay que

qué más elementos hay importantes donde realmente estamos en rojo y en rojo intenso en toda la innovación en pymes en innovación

en innovación en diseño en innovación en definitiva no tecnológica que es donde tenemos nuestro programa que ya lo estamos atacando y donde hemos puesto en marcha la experiencia piloto del pasado año el programa hazinnova luego

medidas sobre la mesa para que eso sea una realidad sin embargo hay un elemento

distorsionar un poco esa medida porque si se va usted al cuarto bloque tras esos malos resultados en innovación en pymes el resultado que hace referencia a pymes que

y que introducen en el mercado productos y servicios novedosos estamos en verde intenso de hecho en la posición catorce de todas las regiones luego parece que también hay una cierta distorsión entre esos resultados y habrá que analizarlos más en profundidad no obstante ahí

y si realmente hay productos y servicios en el mercado que nos hacen ser una región de altísima innovación porque estaríamos en el puesto catorce y

de propiedad intelectual estamos bastante bajo no estamos en rojo pero estamos en rosa significa que nuestras empresas tenemos que ayudarles a que todos esos nuevos productos y servicios además

los patenten y los registren luego hay elementos en los que hay que trabajar y hay que trabajar

las pymes y desde luego el que tanto públicos como privados subvencionemos más esa innovación que es una innovación de riesgo la previa a la puesta en mercado

son los dos ejes sobre los que tenemos que trabajar de forma muy intensa que el factor de estado nos va a seguir haciendo daño

estamos mejorando en innovación pero hay que continuar y hay que continuar con un pulso mayor como usted misma lo decía el lehendakari lo ha dicho en multitud de ocasiones

pedido no exigido lo diría en muchas ocasiones en foros empresariales decir necesitamos más inversión empresarial necesitamos continuar

y hay que continuar en ese sentido yo creo que el tejido empresarial tiene que ser consciente de que nuestros programas son de ayuda y desde luego todos los programas

hasta los más vamos a decir más intensivos

y subvenciones como son los hazitek tanto estratégicos como no estratégicos dirigidos al tejido productivo se están utilizando y se están utilizando bien pero tenemos que continuar en ese sentido el compromiso y me va a perdonar la corrección del cinco por ciento de incremento es compromiso de gobierno

ustedes habían puesto como exigencia el tres por ciento en el dos mil veinte eso es cierto

por tanto vamos a continuar no nos conformamos con el cinco por ciento tenemos que intensificar más las ayudas que estamos obteniendo europeas están ya casi en el límite

si las ayudas del estado pasan a ser lo que deben ser subvenciones la parte pública yo creo que puede mejorar sustancialmente pero no es suficiente piensen ustedes que la parte pública llega a ser un veinticinco por ciento treinta por ciento como máximo del conjunto de lo que se invierte en el estado en el estado en cualquier país y en cualquier región quien tiene que hacer de verdad es el esfuerzo es el tejido

llegar hasta la última llegar perdóneme la expresión hasta la última milla

tecnológica y no tecnológica y demos también impulso a esas otras actuaciones que son relevantes intensificar desde luego sectores que van a ser

tenemos que continuar los resultados de una estrategia como puede ser basque industry cuatro punto cero o una estrategia de cambio climático no obstiene resultados a corto plazo pero no por ello tenemos de repente dar un golpe de timón

creo que desde el consejo vasco de ciencia tecnología e innovación se hace un esfuerzo en analizar dónde estamos cómo vamos mejorando dónde están nuestras debilidades y dónde tenemos que continuar

de cuáles son los resultados y cuáles son nuestras debilidades porque eso marca la línea estratégica a la que tenemos que ir a futuro

compromiso de gobierno incrementar ya en el año dos mil veinte lo ha dicho el lehendakari las partidas presupuestarias dedicadas a la innovación y continuar en nuestro esfuerzo en la dedicación a esas pymes a las que no conseguimos llegar todavía no podemos tener

ahí están nuestras debilidades y ahí tenemos que atacarlas eskerrik asko eskerrik asko tapia anderea

aukera hobeago batean gaudelako pero además porque entendemos que hay una cuestión

la dirigíamos directamente al lehendakari porque entendemos que cualquier otra visión que sea de silo que tratemos de compartimentar que el problema está únicamente en un entorno no es una respuesta adecuada esa también y esa era la partida también del porqué de la pregunta

y aun sabiendo y compartiendo como ha expuesto la señora tapia cómo se computa

no siendo real con lo que están invirtiendo las empresas seguimos teniendo el mismo problema porque cuando hacemos el computo conjunto

con el objetivo de llegar al dos mil veinte al tres por ciento el último dato era un ochenta y dos un ochenta y cinco había remontado un poco por debajo del dos por debajo de la media europea muy alejado de las regiones de cabeza y hablo como región no hablo del estado con lo cual la suma sigue siendo negativa sabiendo

favorable en uno negativo en otro y que el problema sigue siendo de fondo efectivamente tenemos varios graves problemas pero incluso si fuesemos

que no tenemos un resultado malo también se nos vuelve a ocurrir que fundamentalmente se produce entre

formación previa y además dentro de los sectores tecnológicos también en las empresas que son medidas grandes con lo cual nos volveríamos a encontrar con el mismo problema que tenemos

diferentes formas jurídicas de esas empresas y esas son diferentes contribuciones al país

tenemos que plantear por eso que la naturaleza de cada empresa también determina en qué elementos son fuertes y cómo llegar hacia ellas y creemos que eso es otra de las cuestiones que también se tienen que abordar no estamos hablando solo de pymes estamos hablando también

ingresos públicos las pymes en proporción pagan más impuestos el valor medio

el impuesto de sociedades y cooperativas y sociedades laborales también tienen mayor incidencia también luego

de nuestra sociedad qué no decir de los centro especiales de empleo y empresas de inserción

porque ni todas las oportunidades están al alcance de todos ni todos contamos con las mismas capacidades y conocimientos necesarios para hacer ese tránsito

ante la capacidad de lograrlo o no y creo que esa es la reflexión que tenemos que hacer como país porque nos seguimos planteando somos un país innovador este va a ser un gobierno innovador va a plantear

pero qué planteamiento se está haciendo en consonancia con lo que se está haciendo también en los ámbitos por ejemplo de la industria cuatro punto cero

y sin embargo todos tenemos que llegar a la misma meta pero la cuestión es que aquí los cambios

son disruptivos no son cambios graduales lo que decíamos es que se ha conseguido seguir adelantando seguir avanzando sí pero es que no se está planteando cambios disruptivos cuando sin embargo el cambio real global está siendo disruptivo

con nuevas tecnologías que cambian las reglas de juego eta gogoeta horretan gap hori

hitz egitera beraz ez da ni silos ni compartimentos en este caso es un análisis que se viene haciendo además le voy a decir no hemos hecho el análisis de este informe

analizando dónde estamos cómo vamos evolucionando y no solo en función ris que nos saca europa cada dos años sino de un propio análisis que hace el gobierno en función de los puntos débiles que detectamos para ver cómo vamos evolucionando y es algo que nos preocupa y nos ocupa y por eso se van estableciendo nuevos instrumentos

de la administración vasca que es desde luego la que depende de nosotros ahí estamos de acuerdo el que tenemos que incrementar y que no nos podemos quedar no nos conformamos

y es cierto que es objetivo de todos pero también es importante cuando hablamos de públicos y privados diferenciar qué hace cada uno porque en muchas ocasiones podría entenderse que la parte pública dado que sale en rojo resulta que no es

sí existe una apuesta y real y hay que explicarla muy bien pero nosotros seguimos apostando ahora incrementando la apuesta a futuro lo ha dicho el lehendakari y no lo voy a volver a repetir pero intensificando además

y ahí tenemos que dedicarnos a introducir nuevo equipamiento a través de programas de renove

que realmente se está haciendo un esfuerzo muy importante y voy a poner también sobre la mesa una iniciativa que

en esta legislatura el pasado año que es el centro de ciberseguridad el centro vasco de ciberseguridad donde trabaja a parte de

también desde seguridad con elementos novedosos y elementos desde luego que son disruptivos

es que ahí está nuestra debilidad y nos tenemos que centrar en las debilidades si queremos mejorar creo que estará de acuerdo conmigo seguro que podemos mejorar en todo pero donde están nuestras debilidades es donde tenemos el margen de mejora y ahí nace el programa hazinnova donde queremos llegar

muy concretas pequeñas que permitan dar ese salto cualitativo en innovación y un compromiso con el posicionamiento como región innovadora tenemos que continuar además teniendo relación con otras regiones innovadoras que nos permitan hacer ese crecimiento más rápido el terreno de juego es europa estoy de acuerdo y a mí me encantaría estar en color azul marino que es el color

en ese mapa pero para eso tenemos que hacer muchísimas cosas y no solo nosotros y tenemos que trabajar de forma conjunta como siempre lo hemos hecho en euskadi de forma pública y privada

que por cierto además de ese famoso no está el señor

además de ese pincho es algo que nos dispone o nos predispone a mejorar por tanto eso es lo que nos tiene que predisponer a mejorar y a llegar a ser azules marinos en ese color pero desde luego lo que nos toca es

no solo al gobierno a todos y cada uno de los diferentes agentes y creernos que esto es una realidad para poder llegar a ese verde porque es posible es posible los recursos son

sea una realidad y permítame discrepar porque usted sabe mucho de esto pero

es otra cosa es aquello que ocurre entre que ponemos las subvenciones a la innovación hemos llegado a un prototipo y aquello llega al mercado y ahí es donde no hay subvenciones

hay muchísimas herramientas del gobierno que se pueden utilizar qué ocurre que en muchas ocasiones con las subvención hemos llegado al prototipo y quizás el tejido productivo no quiera hacer ese esfuerzo y lo tienen que hacer ellos

es eso o en una startup cuando necesita el crecimiento cuando desde una idea ha puesto en marcha una empresa y necesita poder crecer y creo que ahí

bai eskerrik asko lamentablemente volvemos a hablar de los alardes de irún y hondarribia porque nuevamente la sociedad vasca tendrá que asistir perpleja a una situación que es anacrónica y absolutamente

no han dado la cara verdaderamente para defender sin fisuras los derechos de las mujeres la vulneración del derecho

expresión máxima más clara explicita y sin complejos de la discriminación de las mujeres por el mero hecho de ser mujeres en el espacio público que es el espacio de todas y todos sin excepción aquí señor urkullu está sucediendo algo muy grave

llevan años siendo abanderados del machismo y la discriminación mire la historia les va a poner en su sitio el futuro es feminista

que las feministas tenemos memoria llegaremos a un tiempo en el que miraremos atrás y recordaremos incrédulas el papelón que están haciendo ustedes en los ayuntamientos de irún y hondarribia

para resolver esta situación injustificable el gobierno vasco envía a la directora de emakunde para que parezca que apoya a los alardes igualitarios y cada año la señora landaida es increpada año tras año su gobierno manda a dar la cara a una mujer debe ser cosa de chicas es increpada por ser mujer y sabe porque es increpada porque ustedes están respaldando una alcaldía unas alcaldías que aplauden animan y promueven la discriminación de las mujeres y ya para rizar el rizo el año pasado la consejera de educación en un gesto personal pueden decir que lo personal es político

ustedes evitan pronunciarse porque tiene miedo a perder votos acaso en estas localidades

pasa el alarde igualitario se podía escuchar todavía hoy estamos asimilando lo que hemos conseguido este año en el que hasta hace poco solo tenían cabida los hombres si se nos da apoyo y visibilidad podemos seguir creciendo

estas palabras podían ser de cualquier niña adolescente

o hondarribia que sueña con un solo alarde público democrático e igualitario pero no todavía no

en su pueblo irun el señor santano acompañaba a las jugadoras de fútbol a tres mujeres que representan a tantas otras que han sido históricamente discriminadas excluidas e incluso increpadas por querer participar en una actividad

por qué participaba de ese acto y esa foto el señor santano

señor lehendakari serán capaces los partidos que sostienen al gobierno es decir el pnv y el pse de terminar con el ninguneo que hacen a los derechos de las mujeres

continuarán siendo cómplices de la discriminación que pasa en los alardes y usted

con su ausencia está habilitando los gestos discriminatorios de las alcaldías de irun y hondarribia nos vemos

señora arana le reconocería más si fuera usted un poco más humilde y reconociera además usted también que ustedes tuvieron que retirar un cartel de nosotras como partido político a qué viene la crítica ya que usted me dice a qué viene esto a qué viene esta crítica al gobierno

le invitaría a que dentro de lo que es el arco de responsabilidad municipal me permite por favor

gracias dentro de lo que es el ejercicio de la responsabilidad municipal le agradecería que

más allá de lo que es la representación del partido nacionalista vasco y partido socialista de euskadi a lo largo de la historia para también enjuiciar

antes incluso que las del partido nacionalista vasco en alguno de los municipios en todo caso el apoyo del gobierno vasco a los alardes igualitarios es inequívoco

todos los años y la dirección de emakunde no es porque sea una mujer es la dirección de emakunde que depende del lehendakari y no solamente la dirección de emakunde sino también la secretaría general de derechos humanos y convivencia en los foros de dialogo promovidos por la diputación foral de gipuzkoa

y nuestra actitud ha sido siempre propositiva tal y como recoge la ley nuestra responsabilidad es impulsar asesorar planificar y evaluar

en conjunto no se ha conseguido el objetivo por lo tanto

en cada localidad desde su propia realidad su marco y protagonistas propios

desde hace más de veinte años y la solución duradera solo vendrá de la mano del diálogo constructivo para posibilitar el entendimiento nos encontramos ante una nueva oportunidad las nuevas corporaciones municipales y la institución foral

y en ese sentido reconocemos los movimientos de diálogo entre representantes de los distintos alardes los procesos de cambio deben producirse en las mismas localidades en cada municipio desde su realidad y con su propia vía

único camino válido para solucionar este conflicto las instituciones supramunicipales tenemos un papel activo en impulsar y asesorar para favorecer soluciones

en el marco de nuestras competencias señora arana necesitamos algo más una actitud constructiva por parte de las instituciones y agentes de las propias localidades en otros casos se ha logrado avanzar adaptando tradiciones que nacieron en contextos diferentes la implicación de la ciudadanía ha enriquecido

está claro señora arana que la solución duradera no vendrá por imposición y por la presencia o no presencia del lehendakari en un alarde sino a través del diálogo y del consenso es la vía que seguiremos impulsando entre las nuevas corporaciones y los agentes implicados desde el máximo respeto

muchas gracias señora presidenta señor lehendakari se están constituyendo las nuevas diputaciones forales

de unos más que de otros pero se conocen ya de hace tiempo lo cual es una ventaja además de pertenecer al mismo partido político hay varios asuntos que nos atañen tanto a las diputaciones al gobierno vasco incluso a los ayuntamientos sobre todo en los que atañen a la financiación por eso

y teniendo pendiente una reforma del irpf desde hace más de dos años

para poner en marcha las reformas que hacen falta en estos momentos eskerrik asko damborenea jauna erantzuteko lehendakari jauna zurea da hitza

efectivamente la coordinación política con los mismos criterios que hemos mantenido hasta la fecha diagnóstico y estrategia compartida colaboración

armonización transparencia y eficiencia y entre las cosas que tenemos también como ámbito de trabajo y no porque sea el mes de julio o estemos en verano

como también al presidente o la presidenta de eudel

también para una labor coordinada entre el conjunto de las administraciones eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna damborenea jauna zurea da hitza

muchas gracias señora presidenta señor lehendakari me alegro mucho que ya tenga previsto reunirse

porque es evidente que la ley de aportaciones aparte del retraso que tiene

cosa que sería impensable que las diputaciones o los ayuntamientos pudieran hacerlo cuando la propia ley municipal otorgó competencias nuevas a los ayuntamientos a los que les falta

que eso es evidentemente una de las urgencias que tiene este país por otro lado yo quiero recordarle que

sí se hizo la del impuesto de sociedades nos queda pendiente la del irpf de la que hablamos ya hace dos años

que cuando usted se reúna con los diputados generales lo que les plantee es para bajarlo no para subirlo ese era el planteamiento con el que nosotros hablamos y negociamos

hace más de dos años yo solo le voy a pedir una cosa que es que fije las prioridades

a ver no es lo mismo pactar con bildu o con el partido popular planteamos cosas diametralmente distintas y a un gobierno y a un lehendakari se le puede pedir y plantear

unas preferencias y unas prioridades no puede ser que al señor lehendakari le dé todo absolutamente igual

si el planteamiento va a ser en el sentido que estamos planteando nosotros y que planteamos ya en su día o va a ser en otro

sí le diré una cosa y siguiendo las palabras de la señora tapia que quería llegar al azul marino le recomiendo a usted que venga

y deje el rojo y los números rojos para otros y evidentemente

en este caso bajar el irpf eskerrik asko danborenea jauna lehendakari jauna zurea da hitza

vinculada también a lo que es el trazado del tren de alta velocidad al cupo etcétera en cualquier caso quiero recordarle que el gobierno vasco y las diputaciones forales coparticipamos en más de cincuenta órganos de relación interinstitucional y que vamos a dar continuidad a esta política de coordinación que está dando resultados positivos compartimos una misma visión de los retos y las prioridades del país crecimiento económico y empleo cohesión y justicia social son muchos los ámbitos efectivos de colaboración

un fondo de compensación que permite distribuir los recursos de mutuo acuerdo y además facilitará la renovación de la ley de aportaciones a la que usted hacía referencia en la que estamos trabajando de conformidad con los acuerdos del once de octubre en el consejo de finanzas del once de octubre del año pasado en el ámbito económico

la reactivación de las zonas desfavorecidas y los planes comarcales de empleo

invocado en las dos intervenciones anteriores hemos impulsado el consorcio de internacionalización y desarrollamos la estrategia de parques tecnológicos en el ámbito social por ejemplo estamos comprometidos con los planes de igualdad los planes de juventud o el plan vasco de migración hemos acordado medidas de apoyo a las familias y la conciliación

participamos en el proyecto universidad más empresa el consejo de formación profesional formación dual y apoyo al emprendimiento y en esta nueva etapa

porque la experiencia de los últimos cuatro años considero que ha sido fructífera la experiencia de colaboración y coordinación creo que además de fructífera

eficaz altamente especialmente en el ámbito quiero hacer referencia a que en el ámbito de la armonización fiscal a través del órgano de coordinación tributaria

mantendremos como he dicho un encuentro con las nuevas diputaciones forales para compartir diagnóstico y seguir trabajando en la nueva etapa y uno de los temas a abordar reitero es el que pueda ser la nueva ley de aportaciones

usted ha hecho referencia a una única figura impositiva yo creo que tenemos la tarea de hacer la evaluación de los resultados de la reforma fiscal en su conjunto tomando también la referencia de cada una de las figuras impositivas en definitiva vamos a afrontar los retos de país mediante la colaboración interinstitucional porque forma parte

sobre una cuestión sobre la que ya le pregunté en noviembre del año dos mil siete porque seguimos pensando que ustedes del año dos mil diecisiete cierto porque seguimos pensando que ustedes vienen incumpliendo los acuerdos a los que alcanzan con los sindicatos en la empresa

en torno al mantenimiento de la plantilla estructural del mantenimiento de las unidades móviles de los trenes son ya nueve años de incumplimiento no solo de las reivindicaciones de los sindicatos sino de los acuerdos

han firmado en diferentes ocasiones la última hace tres días a las puertas de los tribunales ante la demanda de varios

que van a cumplir lo que en anteriores ocasiones ya firmaron que iban

a cumplir entienda que la desconfianza desde luego la de nuestro grupo es mayúscula en el año dos mil diez

ya hace nueve años se alcanzaron los primeros acuerdos sobre esta cuestión y

en una cuestión muy sencilla ochenta puestos de trabajo estructurales en el mantenimiento de las unidades móviles así es verdad eso es lo que se firmó en el año dos mil diez

en junio terminando junio del año dos mil diecinueve y este acuerdo no se ha cumplido no están creadas ochenta plazas estructurales en el mantenimiento de las unidades

posteriormente como no se cumplían estos acuerdo y ya sé que usted se conoce bien la historia pero creo que es mi obligación de hacer el relato de lo que desde luego en nuestra opinión

en el año dos mil catorce dos mil quince ante ese incumplimiento esta cuestión llegó a este parlamento en la anterior legislatura y este parlamento aprobó

se instaba a cumplir una serie de cuestiones entre ellas que se ejecutará de una vez las ochenta plazas estructurales pasaron los años y no se han creado aquel mismo año

y que incluía la creación de esas plazas estructurales con una fecha concreta que era la del año dos mil dieciocho año en el que se comprometían a tener ya sacadas las plazas al menos si no recuerdo mal el noventa por ciento de ellas setenta y dos plazas esto sigue sin haberse cumplido

le pregunté como le decía en el año dos mil diecisiete por qué no se había cumplido y si se iba a cumplir usted me dijo varias cosas entre ellas

y usted me dijo que es los presupuestos del año dos mil dieciocho

para crear esas plazas efectivamente la partida estaba y efectivamente estamos ya en el año dos mil diecinueve

porque las plazas no se han creado yo le dije en aquella ocasión que

a resolver en el año dos mil dieciocho esa cuestión y que los sindicatos a pesar de que ustedes acordasen con ellos también pensaban lo mismo

los sindicatos habían acabado con las movilizaciones y no nos equivocamos en nuestro grupo parlamentario las movilizaciones han vuelto porque ustedes no cumplen y los sindicatos

una gran paciencia y sobre todo una enorme voluntad de diálogo con este gobierno los sindicatos creo que están viendo

año tras año en aquella ocasión también usted me dijo que en el futuro

diferentes escenarios posibles nosotros creemos que ustedes ya están resolviendo sobre los escenarios han vuelto a sacar una licitación recientemente en mayo

varias de las tareas de mantenimiento de unidades móviles y solamente

porque les han puesto una demanda en nuestra opinión es grave que los sindicatos tengan que demandar a la empresa a una empresa pública por incumplimiento de acuerdos

sino que estamos hablando de que reclaman que se cumplan los acuerdos acuerdos además que en este caso vienen recogidos en el propio convenio colectivo como usted sabe también perfectamente nosotros pensamos que detrás de esto lo que hay es el modelo privatizador de su gobierno una privatización

sigilosa que la vemos en otros sectores pero que la estamos viendo en la empresa

previamente se hizo con otros servicios de la empresa limpieza seguridad

ya sé que no compartimos ni visión ni siquiera lenguaje ya sé que ustedes esto no le parecen privatizaciones ya sé que ustedes nos hablarán de externalizaciones para nosotros

sigilosa en este caso de la empresa pública

trabajadores de empresas externas realizan trabajos que podía hacer la empresa perfectamente con sus operarios y manteniendo esa plantilla estructural que ustedes han comprometido y que no ejecutan la podría hacer la empresa

externos eso sí en estructuras públicas y en talleres públicos pagados con dinero de todas mientras tanto los trabajadores propios de la plantilla pierden carga de trabajo nosotros pensamos que esta es la estrategia

que no va más allá porque se encuentra con la oposición de los sindicatos que no solo defienden sus condiciones de trabajo y sus derechos que así es sino que además están defendiendo un servicio público y que pueda ser mantenido con trabajadores públicos que están perfectamente preparados para hacerlos con trabajadores de una

pública a nosotros lo más grave que nos parece es que ustedes ahora a puerta de los tribunales han llegado a un nuevo acuerdo que no va a garantizar en caso de que cumplan que se creen las ochenta plazas a las que se comprometieron desde luego antes de dos mil veinte estamos hablando ya señora

de una década creo que estamos hablando de una década desde que el gobierno aseguró que iba a garantizar esas ochenta plazas estructurales y no se garantizan nosotros por lo tanto creemos que usted en este asunto concreto y la dirección de euskotren con usted

no tienen palabra porque han incumplido demasiadas veces por lo tanto yo con esta interpelación la verdad

no espero gran cosa porque yo no tengo ninguna garantía de que vayan a cumplir un nuevo acuerdo cuando han firmado un montón de acuerdos que no cumplen sobre la misma

es que reconozcan ustedes que llevan nueve años incumpliendo acuerdos el último aquel de dos mil quince al que he hecho referencia hablaba del año dos mil dieciocho para tener esas setenta y dos de las ochenta plazas creadas y no está hecho yo le pido a usted que al menos reconozcan que no que le digan a los trabajadores que no han cumplido si es que su mensaje es que finalmente van a cumplir desde luego yo no tengo ninguna confianza en eso

que no han cumplido porque aquí lo que está pasando es que tenemos una empresa pública que tiene y podría tener aún una capacidad mayor suficiente para mantener el mantenimiento de las unidades móviles con personal propio y se está haciendo a través de trabajadores externas algunos de los trabajadores se van a ir jubilando y no tenemos garantía de que esas plazas vayan a ser cubiertas y sobre todo se está haciendo en mi opinión con engaños con demasiados engaños porque son muchos años

a una década si ustedes quieren reducir el personal

externo al menos díganlo y sean sinceros con los sindicatos

con nuevos acuerdos en los que se recoge prácticamente lo mismo eskerrik asko hernández jauna

de empezar un par de aclaraciones que creo que es importante estamos hablando de euskotren que es el operador ferroviario y me hablaba usted en un momento de mantenimiento de infraestructura y es por no equivocarnos la infraestructura

bueno para contestar a su interpelación voy a hacer referencia a tres aspectos que creo que es importante analizarlos así como usted me ha hecho historia yo creo que también es importante analizar este tema desde el punto de vista presupuestario desde el punto de vista laboral y desde el punto de vista normativo en primer lugar tal como le dije en su momento en el año dos mil dieciocho

concreta que decía cumplimiento acuerdo mantenimiento material móvil ferroviario que pretendía

que por cierto está recogida en el acuerdo del convenio colectivo en los últimos años sí es verdad que la empresa ha ido comprando diferentes unidades móviles unidades móviles

han sido diferentes pero en cualquiera de los dos casos yo creo que hay unas que son las denominadas novecientos y otras las denominadas novecientos cincuenta que al efecto son

nuevas unidades donde aparecía que dado que eran tecnológicamente avanzadas durante la primera fase el mantenimiento a corto plazo vamos a decir se iba a realizar dentro del contrato

se recogía así desde esos años de dos mil diez posteriormente en el veinte mil ciento veinticinco pero bueno fruto de esa tensión que existía porque

y que se pensaba que quizá a largo plazo también iba a ser bajo contrato

se instó al gobierno vasco a cumplir debidamente con ese compromiso de cubrir esas plazas estructurales esas ochenta plazas estructurales y en respuesta a esas indicaciones de ocho de junio de dos mil quince de este parlamento a pesar de que no era yo la responsable

que a partir del año dos mil dieciocho y una vez finalizada el contrato de mantenimiento de la serie novecientos es decir cuando se alcanzara ese corto plazo de mantenimiento el ciclo largo de mantenimiento se realizaría con esas personas

el número de plazas vacantes existentes era de veintisiete y eran las plazas que había que poner en funcionamiento y deberían ser cubiertas y no hacemos referencia a doce jubilaciones adicionales que existían a finales del año dos mil diecisiete porque

la puesta en funcionamiento o la renovación de esas plazas pero presupuestariamente existían

las veintisiete nuevas es verdad y también se recoge así

se preveía que debido a todo el procedimiento que hay que realizar

se iban a contratar en el último trimestre por tanto la partida presupuestaria que se recogía no era la completa sino que era únicamente la que hacía referencia a ese trimestre de ahí que cuando vamos a la prórroga de presupuestos para este año dos mil diecinueve nos encontramos con que no pueden salir las plazas

puesto que tenemos dotación presupuestaria de únicamente una cuarta parte de las necesidades para cubrir esas plazas sin embargo como consecuencia del acuerdo

leyes presupuestarias de carácter urgente que se aprobaron a partir

para poder sacar esas plazas desde la dirección de presupuestos en ese momento se nos habilita esa partida y tenemos ya la partida completa presupuestariamente es importante analizarlo porque

actuaciones y que jurídicamente se encuentren soportadas presupuestariamente también han de ser soportadas de lo contrario no pasan los trámites correspondientes en cuanto a aspectos laborales

de acuerdo con la normativa vigente en euskotren también

convencional que hace referencia a cómo se cubren

y a tal efecto se comienza estableciendo el orden de cobertura en función de una serie de parámetros que hay que acordar con los trabajadores desde el acoplamiento de víctimas de violencia de género

lo recogido en ese precepto en el año dos mil dieciocho en el convenio colectivo se comenzó el proceso de cobertura de esas vacantes atendiendo a ese formato y para cumplir dicha orden de una forma

acordando las plazas que debían ser cubiertas de los listados resultantes de las convocatorias y atendiendo a la petición de los responsables y tras dar respuesta a diferente situaciones que organizativamente había que atender se acordó no antes del catorce de febrero de este año dos mil diecinueve la cobertura de cinco vacantes estructurales de técnicos de mantenimiento

cubriéndose de forma íntegra la lista generada por la convocatoria que ya salió además de acuerdo con lo que establece ese artículo catorce hay que poner en marcha una serie de análisis de aptitudes médicas

dado que es una empresa ferroviaria de servicio ferroviario también deben ser asumidas

este mismo mes de junio se han pasado todas esas pruebas y que actualmente se está cumpliendo con ese procedimiento qué más pues evidentemente para cubrir todas esas veintisiete plazas además las acordadas de cobertura

existen una bases de convocatoria de esas plazas que se han presentado también

y que en este momento nos toca cubrir en cuanto a aspectos normativos para poder cubrir esas plazas hay que proceder a una

conoce y en este mes de mayo de dos mil diecinueve se ha procedido a contratar a la empresa tea cegos para que aborde toda esa cobertura dado que

de las vacantes por una parte la de las jubilaciones y esas cinco seis plazas más

los pasos sí es cierto que administrativamente es complejo que la situación presupuestaria

es de continuar haciéndolo de lo contrario no hubiéramos adjudicado ese contrato para poder dar cobertura

a esas vacantes es cierto insisto que se ha retrasado y como consecuencia de la prórroga presupuestaria se ha retrasado más de la cuenta pero

y que se va a proceder desde luego a cubrir esas plazas de la forma más adecuada posible tenemos ya esa licitación en marcha

cubiertas de acuerdo con ese procedimiento más y quiero insistir daremos cobertura a las plazas de jubilaciones que en el dos mil diecisiete eran doce

y desde luego en este momento yo personalmente lo desconozco pero la empresa seguro que lo conoce y

dieciocho se acordó con la parte sindical que habría que analizar

externa de esas plazas y que ambas partes sabíamos que era imposible que en el año dos mil dieciocho fuera posible cubrirlas era noviembre no obstante a pesar de todo ello se ha puesto en marcha todo el procedimiento y se va a continuar con ello para dar cobertura a esas plazas y cumplir con la plantilla estructural de las ochenta personas y dar cumplimiento a lo que este parlamento exigió

sí señora consejera yo soy consciente de que usted no ha estado al frente en la responsabilidad de este asunto desde el principio y yo no le voy a atribuir a usted responsabilidades de sus predecesores pero para nosotros desde luego es muy importante

demasiado de su respuesta en esta interpelación porque ya hace dos años ustedes me vinieron a decir lo mismo no no estamos haciendo las cosas para que se cumpla y yo le estoy hablando de una cuestión para que haya

en una empresa pública que tiene ahora alrededor creo

para cumplir esto una década hombre yo puedo entender que quien me siga a mí también en mi grupo en la oposición pueda seguir preguntando al gobierno a quien le siga a usted

y que por lo tanto cumplen los acuerdos los acuerdos no se han cumplido el gobierno no lo personalizo en usted en lo que no le corresponde sí en lo que le corresponde el gobierno

las trabas no son tantas si se tiene voluntad porque crear esas treinta

no me diga usted que es una cuestión tan complicada técnicamente no es una cuestión tan complicada técnicamente efectivamente hay que hacer una serie de cuestiones

con ustedes para abordar también esas cuestiones y el gobierno lo que está haciendo es continuamente retrasando esta cuestión en el tiempo

nosotros mantenemos la tesis política

que prefiere otro tipo de gestión de lo público y además creemos que los sindicatos desde el año dos mil diez también están coincidiendo con esta posición

me aclara me explica que los talleres no son de euskotren

pero son talleres también públicos pagados con dinero público

infraestructura construida con dinero público y pagada con dinero público donde están trabajando

de empresas externas por lo tanto es un servicio

está externalizado y para nosotros la externalización de gestión sostenida en el tiempo de servicios públicos es una privatización más allá

siga siendo pública faltaría más si no sería una privatización completa sería el modelo defienden otros que están aún más a la derecha que ustedes pero a nosotros en esta cuestión sobre todo lo que nos preocupa y eso es lo que yo sí esperaba al menos de esta interpelación es que el gobierno reconozca que no ha cumplido hasta ahora los acuerdos a los que ha llegado con los sindicatos

dificultades técnicas porque hay dificultades presupuestarias que eso

que hasta ahora no han cumplido porque si no es muy difícil fiarse de ustedes cuando dicen que ahora sí van a cumplir y que ya está el procedimiento en marcha y que a partir del uno de noviembre saldrá

y que nos iremos a dos mil veinte y tal vez a dos mil veintiuno es muy difícil confiar en un gobierno que incumple acuerdos y que ni siquiera es capaz de reconocer que no ha podido cumplir esos acuerdos porque esa es la realidad hoy en día esas ochenta plazas

de dos mil diecinueve y se puede argumentar lo que se quiera se puede argumentar dificultades de todo tipo pero al menos hay que reconocer la realidad y la realidad objetiva

de que sean esas ochenta plazas estructurales desde el año dos mil diez estamos hablando de una década y a mí eso me parece importante

eskerrik asko presidente andrea señor hernández en la tesis política no vamos a entrar porque creo que no es

al menos a lo que me ha correspondido a mí como responsable de este departamento y por tanto responsable de euskotren en este momento los contratos de las unidades tenían una determinada forma es decir contratar a las unidades y además un mantenimiento a corto plazo y es verdad que se acordó

aceptado y para ello había que establecer y analizar cuáles eran las coberturas de las plazas que había que hacer veintisiete en el año dos mil diecisiete que es con lo que se elaboran

creo que más compromiso que establecer en el presupuesto que esas plazas se van a dotar no puede existir

cobertura de determinadas plazas y en este caso plazas que no están dotadas la cobertura de plazas vacantes se hace por existencia de crédito además de todos los aspectos laborales que hay que acordar en convenio además de todos los aspectos jurídicos

creo que el compromiso se demuestra ahí dos mil dieciocho

sí es verdad que no se pudo ejecutar dado que era el final y en ese sentido nos hemos retrasado ahora bien qué es más importante reconocer ese retraso o que

en el camino para poderlas dotar creo que lo segundo dos mil diecinueve existe una dificultad puesto que nos encontramos en prórroga presupuestaria y podría haberse quedado

la misma situación y dotando únicamente la cobertura para un cuatrimestre hemos hecho el esfuerzo para que en esa ley urgente se cubriera

creo que hemos demostrado también que queremos cumplir ese objetivo han salido ya se han dotado ya cinco de las plazas creo que eso también es parte del cumplimiento y en este momento

para que se pueda realizar la cobertura del resto de las plazas creo que eso también es demostración de que se va a hacer hay dinero y hay proceso en marcha tarde

acordado de acuerdo con todo lo que se rige en el artículo correspondiente

acordado con los trabajadores en la forma de hacerlo creo que más voluntad que esa es imposible demostrar por tanto

en hacer que esto sea una realidad y sí me gustaría diferenciar una cosa porque en muchas ocasiones hablamos de empresa pública y servicio público y creo que es diferente hablar de empresa y servicio en este caso tenemos una empresa pública que da un servicio público y es así

la gran mayoría de las actuaciones importantes relevantes para ese servicio se dan con personal público de la empresa y usted lo conoce relativamente bien eskerrik asko

ni ha calificado ni ha recalificado es una actuación propia del ayuntamiento que ha valorado positivamente la generación de empleo en el entorno y es algo que hemos debatido

necesario en este caso yo creo que el gobierno siempre está a favor de aquellas operaciones que generen recursos que generen empleo y que generen posibilidad de

y además el sector logístico se está convirtiendo en un sector relevante que ordenadamente puede generar riqueza y empleo de todos los niveles desde el empleo de

mayor tecnología hasta el empleo vamos a decir de más baja cualificación pero que también es importante en una zona como

señora consejera yo le niego la mayor esta operación no va a generar ni empleo ni riqueza

la margen izquierda es el paradigma del fracaso de la tercerización de una comarca

un estancamiento de los indicadores socioeconómicos y un mantenimiento de ezkerraldea a la cola la pérdida de la identidad industrial y la pérdida del motor industrial de la comarca

no se va a crear empleo y si se crea riqueza no se va crear para el eskualde se va a crear para la empresa amazon mire esta es una foto de las instalaciones de la babcock no exactamente dónde se va a ubicar amazon

invasora es una especie invasora el problema de amazon es una buena metáfora porque amazon es también una especie invasora pero no es una especie invasora porque venga de fuera los tomates el maíz

xenofobia como alguna vez se planteaba hay empresas que vienen de fuera y son muy bien recibidas

cuando destruyen lo que hay y amazon es una especie que destruye lo que hay va a destruir el comercio

por abusar de los resquicios que ofrece la fiscalidad

en el empleo denunciada en infinidad de sitios por apretar al máximo

que los partidos políticos de este país no están para hacer favores al hombre más rico del mundo para que todavía sea un poco más están para apostar por la generación de empleo de calidad en el sector del comercio y en el sector de la industria y usted

tendrá que tener una visión de lo que quiere para la margen izquierda y en este caso concreto hay un coste de oportunidad porque el suelo es un bien escaso

ezkerraldea y ustedes han hecho dejación porque no entra dentro de sus prioridades y lo décimos una y otra vez tenemos aquí un terreno industrial de la antigua babcock wilcox

que lidere la conversión y la activación de este terreno y la lucha por la atracción de empresas de carácter avanzados

no puede aguantar más logística es evidente que tiene que haber empleos para todo tipo de cualificación pero tiene que haber

y no podemos dedicar los terrenos de carácter industrial que deben ser

a este tipo de cuestiones logísticas porque entonces estamos perdiendo oportunidades ayer
hablamos de centros comerciales de limitarlos en la práctica les favorecen eskerrik asko casanova jauna amaitu zaizu denbora tapia anderea zurea da hitza

hacer favores vamos a hablar con un poquito de propiedad porque parece que estamos no sé regalando el suelo y el suelo en este país no se regala

no es propiedad de este gobierno y no puede actuar sobre él hay suficiente suelo en este momento para las actividades industriales que se vayan a establecer y de hecho incluso

oportunidades en la zona de meatzaldea también tercero una actividad

convive con una terciaria porque en este momento logística por qué no es actividad industrial acaso una materia prima que llega a una industria no viene como actividad industrial

tampoco es lo que era está absolutamente modernizada

nuevos empleos de muchísima calidad luego no vayamos a decir que la logística es de tercer nivel puesto que es algo relevante y desde luego

productivo y si quiere usted debatir acerca del comercio creo que ayer tuvieron ocasión de debatir acerca del comercio ahora no confundamos los planos no confundamos los planos porque creo que estamos hablando de una actividad que se puede establecer en euskadi o en otro lugar

que se genere empleo y que desde luego pueda haber diferentes características y diferentes infraestructuras que quizá se adquieran en euskadi por qué vamos a decir que no eskerrik asko

eta esaten zuen la crisis climática no es un problema ambiental

harrigarria bada ere esaten zuen no es un tema ambiental es político es económico es de salud es de movilidad son conflictos internacionales son migraciones

beste ponente batek esan zuena interesgarria oso baita ere hay que hablar con claridad con dureza

esta es una de las quejas que yo he tenido durante toda la legislatura

el inventario de emisiones de gases de efecto invernadero que publica ihobe cada vez está viniendo con más retraso yo creo que debiéramos acordar que si estamos ante una emergencia climática o si la cuestión del calentamiento climático

debemos acelerar la comunicación de la información de la situación real o lo más aproximada a lo real que tenemos en este momento es decir que no

que recibamos el veintiséis de junio del dos mil diecinueve los datos referidos al año dos mil diecisiete en un momento en que estamos recibiendo todos los datos de europa del año siguiente

desde abril pero ya con dieciséis meses de retraso estén publicados en eustat estos datos eta ez bakarrik

las emisiones de ce o dos equivalentes aumentaron un cinco coma cinco por ciento lo cual es un dato atroz yo creo que hay que decirlo con esas palabras no solo eso sino que es el dato parcial interanual peor en diecisiete años porque nos tenemos que al año dos mil dos para encontrar un dato de esas características también decir que por primera vez desde el dos mil trece

por encima de veinte millónes de toneladas de ce o dos equivalentes con lo cual digamos que la lucha contra el cambio climático de un golpe hemos barrido no sé si el trabajo de cinco años o los resultados por lo menos

con la que yo creo que se resumen bastantes cosas de las que digo esto nos coloca con una emisión per cápita

toneladas por habitante de la comunidad autónoma vasca nos pone en tres puestos peores que el año anterior pero sobre todo nos aleja todavía más de la media de la unión europea que está en ocho coma cuatro toneladas por cabeza emitimos por cabeza ochocientos kilos de ce o dos más que un europeo medio esto nos coloca en el puesto número diecinueve si fuéramos país y nuestros datos fueran consideramos como país

no ha funcionado no ha funcionado porque se aprobó en el año dos mil quince

y los resultados intermedios por lo menos nos colocan en una situación peor

como poco un par de preguntas una o están mal diseñadas y es lo que usted cree o si resulta que la estrategia contra el cambio climático no puede tener incidencia

sinceramente su interés por este asunto y se lo digo sin ninguna ironía es más comparto absolutamente su preocupación por el repunte de las emisiones de gases de efecto

que se ha constatado en euskadi en el año dos mil diecisiete porque la reducción de las emisiones que causan el calentamiento de la atmósfera y que están detrás del cambio climático es uno de los ejes centrales sino el principal de nuestra policía ambienta pero antes de entrar en materia

disposición de los datos de emisiones ya que pese a que

si usted el papel de descubridor de una información que es pública y totalmente accesible

es un registro propio que realiza en departamento de medio ambiente y

distintas fuentes entre otras el balance energético que elabora el ente vasco de la energía

y a partir de ellas elabora las tablas de estadística al inventario que son revisadas y consolidadas por el órgano estadístico del departamento el inventario de gases de efecto invernadero es por tanto

de modo que las tablas elaboradas por nuestro departamento son remitidas al eustat y se publican tanto en su página web como en la de nuestro departamento

han estado disponibles en nuestra página web desde el pasado dos de abril para todas las personas que hayan querido conocerlas los países publican sus inventarios

dos años después del año inventariado en euskadi hemos realizado esta publicación adelantándonos varios meses a esa fecha límite establecida

un escueto documento divulgativo analizando y valorando los datos registrados

usted se refiere constantemente con inventario para su tranquilidad le iba a decir que

en formato bilingüe en la página web de ihobe y de ingurumena pero ya he visto que lo tiene

mejor volviendo a la cuestión central por supuesto que nos preocupa

en dos mil diecisiete los datos señalan que en el país vasco se han incrementado como usted decía un cinco coma cinco por ciento este año

equivalentes un porcentaje similar al del conjunto de españa mientras que en la unión europea también se han incrementado

si se comparan esas cifras con las de dos mil cinco se aprecia que la disminución de gases de efecto invernadero desde entonces es del veintidós por ciento y esto nos sitúa ligeramente por debajo de la senda marcada en la estrategia vasca de cambio climático

que establece un objetivo de reducción del cuarenta por ciento para el año

pero tan importante como el dato bruto es conocer el porqué de este repunte ya que la identificación de las causas del problema resulta esencial para actuar sobre él con eficacia sabemos de partida que el sector transporte representa el treinta y dos por ciento de las emisiones de gases de efecto invernadero atribuibles casi en su totalidad el noventa y seis por ciento al transporte por carretera

el sesenta por ciento lo generan los turismos y el resto el transporte de mercancías pues bien lo que nos indican los datos de dos mil diecisiete es algo que ya veníamos advirtiendo el transporte ha tenido una gran responsabilidad en el incremento en los tres territorios sus emisiones han subido un seis por ciento en todo euskadi

muy por encima del uno coma seis por ciento del conjunto de españa aunque ciertamente hay que decir en la unión europea el incremento ha sido también alto de un siete por ciento

que representa el treinta y tres por ciento de las emisiones y que ha registrado una aumento del seis por ciento aquí aparecen causas exógenas porque es atribuible

el conjunto del sistema peninsular debido a la baja actividad hidráulica de este año creemos que este aumento ha sido excepcional y que el abandono del carbón en los próximos años y una mejora de la producción hidráulica mejorará este registro

de las energías renovables en el mix energético vasco que tenemos que mejorar urgentemente como señaló

al anunciar el nuevo plan territorial sectorial en esta materia

con un incremento del seis por ciento resultado de la mayor actividad del sector de este ejercicio reflejado en una aportación añadida al pib del cuatro por ciento hay que reseñar

en los sectores industriales intensivos y energéticos afectados por el comercio de derechos de emisión fue del uno por ciento y que esos registros suponen una disminución de un cuarenta y dos por ciento desde el año dos mil cinco

integrados por pequeñas y medianas empresas aumentaron sus emisiones un seis por ciento y ahí está

el sector industrial no regulado que constituye el grueso

aunque también refleja un cierto repunte no es significativo dada su baja contribución en el conjunto de las emisiones vascas

el ratio de las emisiones per capitas expresados en toneladas

y ya entonces superaba el valor medio de la unión europea de ocho coma cuatro toneladas por habitante

tenemos un valor inferior a países como bélgica finlandia países bajos y alemania pero más alto que el reino unido italia francia y el conjunto de españa

aunque si ponemos este valor en relación con el producto interior bruto expresado en paridad de poder de compra

el de euskadi fue ochenta y siete en dos mil diecisiete tres puntos más alto que el año anterior pero inferior también al índice del conjunto de españa

de este consejero para dar la vuelta a esta tendencia preocupante

de la atmósfera pues mire la más importante la fundamental

por el hecho de que las competencias fundamentales de intervención en este ámbito

a nuestro departamento es que la lucha contra el cambio climático aunque sea

cero coma cinco por ciento de las emisiones totales de la unión europea

y a todos a las personas a las instituciones

ya sabemos que no somos los culpables

pero somos responsables de poner medidas cada uno de nosotros en intentar controlar esta situación

el abordar este problema tiene que tener una solución multinivel alineando a todos los ámbitos de la administración vasca al gobierno a las diputaciones y a los ayuntamientos con unos objetivos comunes

tiene que tener un tratamiento transversal la crisis climática

sus consecuencias y la respuesta para evitarlas van a afectar a todas las áreas de nuestra vida

y esto supone que debemos de ser capaces de involucrar al conjunto de la ciudadanía en las soluciones y hacerle partícipe también a esa ciudadanía

muchas de ellas tendrán que ser impopulares aunque sean imprescindibles muchas gracias eskerrik asko

comunicar claro que estén el dos de abril de dos mil diecinueve los datos de dos mil diecinueve cuando ha habido años anteriores en los que

del mismo año de referencia o el siguiente ya estaban comunicados los datos

yo creo que no se si podíamos acordar o no que hay que acelerar la puesta a

yo no sé sí vamos a llegar a acordar esto yo creo que es más interesantes los datos de referencia de mil novecientos noventa insisto año de referencia de kioto pero claro ahí

se nos va mucho más no con los datos que tenemos del dos mil diecisiete los últimos publicados resulta que nuestro descenso es solamente de un seis por ciento con respecto a mil novecientos noventa y la media de descenso europea es

con un veinticinco por ciento de bajada con respecto a la unión europea y yo creo que usted una vez más insiste yo creo que el espíritu de lo que se hablaba en el curso de verano es precisamente hablar con esa claridad y con esa dureza de la que le hablaba todo el tiempo

de dulcificar los datos habla de que somos unos emisores pequeños pues yo no entiendo

cuatro coma siete toneladas per cápita la nuestra es nueve coma dos

yo es que considero que estar por encima de la media de la unión europea que ya está muy por encima de la media mundial es ser unos grandísimos emisores otra cosa es que el volumen total

y el volumen per cápita emitido es tan alto como nueve coma dos toneladas no entiendo cómo podemos estar hablando de emisiones pequeñas

cuestiones que quedan ahí encima de la mesa que es y yo insisto en

yo creo que hay un dato que lo cambia todo uno analiza un poco los datos de emisiones y ve

a través del consumo de electricidad el ochenta y seis por ciento de las emisiones totales de gases de efecto invernadero provienen de la quema de combustibles fósiles más o menos un treinta por ciento o un treinta y dos por ciento industria si se suma la electricidad

del transporte más un quince por ciento de la transformación energética si estamos hablando del ochenta por ciento de la emisión de gases de efecto invernadero a través de la quema de combustibles fósiles

yo entiendo y lo dejo como sugerencia también como reflexión de verano que no se puede hacer acción climática en un gobierno que tiene separadas las

y las medioambientales por eso nosotros venimos insistiendo desde el principio de la legislatura que

de una bajada según el clima dos mil cincuenta de una bajada

con lo cual la guía de acción climática del gobierno vasco no puede ser en ningún caso

y si la guía de acción va a ser esa improbable

pues tampoco entiendo que no va a dar tiempo a aprobar esto para nada y que vamos a seguir con clima dos mil cincuenta y

la ley tampoco solucionaba grandes cuestiones eskerrik asko otero jauna

gracias señora presidenta señor otero podremos discutir si lo que estamos haciendo desde el gobierno es suficiente o no pero tampoco podrá negarme que estamos haciendo cosas

porque se lo he comentado en mi primera intervención la lucha contra el cambio climático es y ha sido el leitmotiv de nuestro departamento

y nos hemos empeñado en actualizar el marco normativo medioambiental estamos trabajando en ayuda a administración ambiental que busca agilizar y simplificar la tramitación administrativa pero también

estamos trabajando en la ley de conservación de patrimonio natural que

espero que los proyectos de ambas leyes entren en esta cámara el próximo mes de julio

retomando el intento promovido en su día por el gobierno socialista de patxi lópez

y ciertamente me habla usted de la estrategia dos mil cincuenta y dice usted que ha quedado desfasada la estrategia dos mil cincuenta tiene que revisarse efectivamente

al calor de los objetivos contemplados en la ley de cambio climático que plantea la neutralidad de emisiones en el año dos mil cincuenta y lógicamente para conseguir ese objetivo

la estrategia tendrá que adaptarse a la ley y tendremos que adaptar las medidas

se puedan cumplir la ciencia y los sectores más concienciados de nuestra sociedad nos urgen tanto

y por eso hemos considerado imprescindible el promover esta

que se están desarrollando sectorialmente desde los ámbitos de la movilidad de la energía de la educación etcétera que establezca una gobernanza del cambio climático disponga de herramientas para contrarrestarlo y aplique una disciplina para el cumplimiento

contraídas pero además estamos haciendo muchas más cosas que lo que es el desarrollo del marco normativo estamos impulsando la red

para desplegar cuál es la acción local con perspectiva climática

ayudas como berringurumena para realización de proyectos de investigación y de adaptación climática de los distintos municipios en unas circunstancias

estudios de adaptación al cambio climático que nos están aportando conocimiento para poder tomar decisiones políticas sobre escenarios y proyecciones climáticas tanto en lo que respecta a la subida del nivel del mar

la estrategia de economía circular que estamos tramitando

de las herramientas transformadoras en un sistema de producción y consumo en clave medioambiental con el objetivo

de reducir reciclar y reutilizar aplicando esto a la gestión de nuestros residuos y no solo a los residuos urbanos sino además a los industriales como las escorias de acería logos de papelera o escorias de incineración

o la circularidad de los productos de sectores críticos como el plástico

minerales la incorporación de la perspectiva climática a la planificación territorial en las directrices de ordenación de territorio

y también en el resto de planes que puedan ser tramitados o la apuesta

de vivienda de la comunidad autónoma como ve

no se resuelve ni con el trabajo de un departamento ni con el empeño de un solo gobierno responder a este desafío requiere de un compromiso concertado a nivel mundial si bien es verdad empezando por casa

para fijar los objetivos que nos marcamos y la ruta que debemos recorrer para ayudar a nuestro planeta a salvarlo de nosotros mismos porque en definitiva tenemos que actuar ahora

y todavía si somos capaces de implementar objetivos

medidas estaremos a tiempo muchas gracias eskerrik asko arriola

andrea zurea da hitza gracias señora presidenta señor consejero

de miranda como zona vulnerable a la contaminación por nitratos y la no declaración del sector sur

en comisión posteriormente a respuesta de algunas cuestiones sobre el informe anual del año dos mil diecisiete referente

a la contaminación por nitratos de la masa de agua subterránea vitorial sector oriental dulantzi y occidental estaba su departamento analizando

de vulnerabilidad en la zona de lantarón también dado que

en los últimos años han sugerido la conveniencia

declaración de la zona vulnerable en la masa de agua subterránea del aluvial

dado que no se detecta una mejoría en algunas zonas tras la aprobación del decreto dos mil once el decreto de buenas prácticas agrarias el informe de diagnóstico previo y de propuesta de limitación de esta zona estudia tres zonas la zona norte la zona intermedia y la zona sur

los puntos de referencia y de control mantienen una tendencia decreciente pero con

la zona intermedia con valores nitrato por encima de cincuenta mg l llevan estables nueve años no hay variación

casi todos los puntos de control muestran una tendencia decreciente hay algún punto que está por encima

manteniéndose el valor promedio de los últimos cuatro años por de veinticinco mm

se dio un evento de vertido de compuestos orgánicos por

la química que siempre hemos llamado y que en la actualidad parece que aún se mantienen los trabajos de

y el informe que hacía referencia de dos mil diecisiete el previo a esta declaración dice que estos vertidos indirectamente ejercen una presión adicional

la propuesta de declaración de zona vulnerable según el informe

incluidos los puntos situados en la zona sur

esto es lo que se recoge en la orden de quince de octubre de dos mil dieciocho que se declara la zona norte la zona intermedia y yo señor consejero

la lectura de los datos nos suscita algunas dudas que nos gustaría si es posible que sean aclaradas porque

y por tanto no es recomendable la declaración no es declarada zona vulnerable no entonces yo voy a los datos y me habla de un punto

luego en los otros puntos son veinticinco once coma cinco diecisiete coma nueve

está por debajo la media de veinticinco con lo cual no entra en esa declaración pero claro si yo me voy a las zonas de vitoria

oriental de vitoria pues hay tres zonas que están una en diecinueve coma tres la otra en cinco coma seis la otra en quince cinco

pero se mantienen declaradas como zona vulnerable entonces

que me gustaría que me lo explique porque si no por la tesis que ustedes mantienen

es lo que nosotros modestamente interpretamos y por eso le hago la interpelación

podríamos concluir que la zona vulnerable oriental de vitoria como le decía tiene valores

del aluvial de miranda sin embargo no se excluyen de esta zona vulnerables no es lo que le decía y como le decía anteriormente

que indirectamente también ejerce presión sobre las aguas del aluvial de miranda y entonces señor consejero me gustaría digo si me puede aclarar este término cuál es la razón o las razones por las que las zona sur no se incluye

vulnerable señor consejero también leído el informe

desde antes de dos mil diecisiete estamos trabajando para incluir estas zonas como vulnerables

a la contaminación por nitratos en octubre de dos mil dieciocho publican la orden correspondiente

de dos mil dieciocho de zonas vulnerables a la contaminación por nitratos debería de recoger datos de estas nuevas zonas entendemos nosotros pero es que no hace una sola referencia y me gustaría saber cuál es el motivo dicen en la orden que el plan de actuación aplicable a esta zona vulnerable será el mismo que el que ya existe para la zona de vitoria

y entonces señor consejero me gustaría saber si nos encontramos situaciones semejantes ante dos situaciones idénticas porque si son semejantes e idénticas entiendo que sea el mismo plan pero

gequisa en el año dos mil once constituye una presión adicional que afecta a las aguas subterráneas del acuífero aluvial bajo los campos de cultivo situados al sur del complejo industrial no sería oportuno

adicionales a las del plan que ustedes citan en la orden que es el de vitoria y como última cuestión y

que como dicen siguen los trabajos de remediación de la zona afectada por la contaminación del dos mil once

y de qué actuaciones se habla en ese informe qué están haciendo ustedes

actuaciones quedan para terminar de remediar estos terrenos contaminados cuándo finalizarán estos terrenos una vez finalizado la descontaminación de estos terrenos incluirían

también en el grupo de zonas vulnerables por nitratos

gracias señora presidenta señora lópez de ocariz como usted bien sabe la directiva europea de nitratos de mil novecientos noventa y uno

contra la contaminación producida por nitratos procedentes de fuentes agrarias fue traspuesta en españa mediante real decreto

ya en euskadi en diciembre de mil novecientos noventa y ocho se aprobó el decreto que dictó normas para la declaración de zonas vulnerables

en la disposición adicional del decreto se designó como zona vulnerable el sector oriental de la unidad

en dos mil ocho y dos mil nueve se amplió el ámbito de esta zona vulnerable a los sectores y sector occidental foronda uno y dos el plan de actuación

en una orden que sigue en vigor finalmente en el ámbito normativo en octubre pasado se aprobó a instancias del departamento de desarrollo económico e infraestructuras

la orden a la que usted se refiere y en ella se declara como zona vulnerable los sectores norte intermedio de la masa de agua subterránea aluvial de miranda de esta forma se ha extendido la protección a toda la masa de agua subterránea existente en el subsuelo de la llanada alavesa y de la zona más próxima al ebro

muy intensiva en este contexto las medidas a aplicar en las zonas vulnerables en virtud del plan de actuación

que es controlado por el departamento competente en agricultura y a su vez el seguimiento de las concentraciones de nitratos en las aguas que permita verificar

a través de la agencia vasca del agua en la orden de octubre pasado

se alude ciertamente como usted decía al vertido accidental producido en dos mil once por la empresa general química sa en el polígono zubillaga de lantarón

detallaré lo que se ha hecho para corregir la contaminación causada nada tiene que ver con la

mayor protección a estas aguas subterráneas porque el motivo son los nitratos generados por el uso de fertilizantes en la agricultura y que se filtran al subsuelo los detalles íntegros del expediente

por la empresa que he mencionado tanto en lo que se refiere a la aplicación a la empresa de la normativa en materia de prevención y control integrados de la contaminación

están a su disposición pero hoy voy a señalar los pasos más destacados que se han dado desde nuestro departamento con todo rigor

en enero de dos mil doce entraron en el órgano ambiental los informes de la confederación

y de ura sobre el vertido un vertido que la agencia vasca del agua había detectado el mes anterior

concentraciones significativas de varios contaminantes entre ellos

anilina y benzotiazol y su presencia se detectó también

de general química desde el veinte de enero de dos mil doce hasta la fecha se han realizado un sinnúmero de actuaciones para el seguimiento y control de la contaminación de las aguas y el suelo empezando por el requerimiento a la empresa para que adoptase medidas para evitar nuevos daños

daños que no se han vuelto a producir se inició así el procedimiento de de calidad del suelo previsto en la ley

de todo el complejo industrial de la empresa y la presentación de unas propuestas de relación para corregir el episodio de contaminación

nuevas situaciones como las ocurridas propuestas que incluían la monitorización de la calidad de las aguas subterráneas en el complejo industrial y su entorno y un análisis cuantitativo de riesgos

y el diseño y optimización de barreras hidráulicas para proteger el aluvial del ebro de estos controles se concluyó que

no superándose los índices de riesgo asumibles en los terrenos exteriores al sur del complejo que actualmente se utilizan como suelos de cultivo

no se detectaron riesgos para la salud humana y los ecosistemas

para el consumo de los vegetales habituales en esta zona agrícola

no se apreció riesgo alguno y también se descartaron afecciones por contaminantes en el río ebro a pesar de ello

para los distintos medios y áreas que se vieron afectados por el vertido que incluía la realización

en al menos tres puntos localizados a lo largo de la llanura aluvial donde se habían registrado concentraciones vertidas todas estas actuaciones se han desarrollado según se estableció y vinieron acompañadas de una primera monitorización de la calidad de las aguas subterráneas en julio de dos mil trece y que continúa en la actualidad

y va acompañada de visitas de inspección desde el órgano ambiental y la evaluación de los resultados se realiza en coordinación con los departamentos de agricultura medio ambiente la confederación hidrográfica del ebro y las comunidades de agricultores

y con la participación de las direcciones de ganadería y de salud pública del gobierno vasco de la confederación hidrográfica del ebro de ihobe y ura se celebró

de general química y su entorno en dicha reunión

hasta ese momento cuya conclusión es que las concentraciones de contaminantes detectados han experimentado

y que la evolución biológica del rio ebro es entre buena

también se informó de que iban a continuar las campañas de control de aguas subterráneas de control de cultivos y de control del estado biológico del río

en campos de cultivo además durante el desarrollo del expediente se han tomado muestras y realizado analíticas en los distintos tipos de cultivos presentes en la zona girasol

en distintos momentos y en todos ellos se ha acreditado la inexistencia de riesgo para el consumidor un extremo que ha sido convenientemente supervisado por el departamento

y la prevención de nuevos episodios como en el control y protección de la masa de agua subterránea de miranda de ebro ha sido extenso y continuo

intervención me ha hecho usted referencia a la situación de concentración

del ámbito del entorno de vitoria me hace usted referencia que la zona sur como tiene valores inferiores

considerada como una zona a incluir en esta zona de restricción y hay otras zonas que manteniendo las concentraciones también inferiores a veinticinco mg l

es que en esos ámbitos hay unas concentraciones inferiores a las que se venían produciendo históricamente en las aguas subterráneas con respecto a los nitratos en fin de alguna forma me ratifica lo que usted me dice que

están dando resultados por lo tanto se ha conseguido que en esas zonas hay unas concentraciones de nitratos inferiores a las que venían siendo históricamente y por lo tanto

pues de su explicación podemos deducir que no está descontaminada esta zona eso es lo que le he entendido

nosotros queremos saber hasta cuándo va a estar estos trabajos

qué previsión tienen ustedes qué protocolo están siguiendo en este caso y nos gustaría saber

seguimiento qué conocimiento han tenido

sabe que hay un problema con la comunidad de regantes si les dejan actuar conforme el proyecto que tienen de modificación del regadío parece que hay limitaciones para poder hacer su nueva

acometida y por lo tanto me gustaría saber eso

contraste de datos cuándo deja de ser una zona vulnerable

sur de miranda con los parámetros que tiene le digo que hay zonas de vitoria que deberían dejar de ser zonas vulnerables entiendo e interpreto por lo tanto eso son los contrastes que yo le digo y que creo

por qué el informe de dos mil dieciocho no hace referencia a estas zonas ya declaradas anteriormente creo que debería tener alguna referencia y no aparece en el informe por lo tanto señor consejero creo que hay cosas en este ámbito que requieren que sean más claro y que aparezcan en los informes que su departamento emite además es que

ámbito por lo tanto el informe de dos mil dieciocho debe de contar con unos datos de inicio de ese control de la zona por lo tanto no entiendo cuál es el motivo por el que no aparece

nosotros queremos saber y nos interesa mucho saber qué plan tienen para

dos mil diecinueve estamos cuál es el plan para terminar de una vez con esta cuestión nada más muchas gracias eskerrik asko lópez de ocariz andrea

gracias señora presidenta primero

en estos sectores de la masa de agua subterránea aluvial de miranda de ebro es la filtración de nitratos procedentes de la actividad agraria

adoptando como consecuencia del vertido accidental que se produjo por la empresa general química

de dos mil once ha sido controlado

y se están llevando a cabo multitud de medidas para evitar tanto la presencia como

por apuntar las últimas actuaciones administrativas el pasado veinte

se ha solicitado a la empresa general química la realización de controles semestrales de las aguas subterráneas que incluyen

y la determinación el laboratorio de la presencia de monoclorobenceno benzotiazol benzotiazolona

reevaluación del análisis de riesgos en el supuesto de que se detectaran valores altos de estos contaminantes algo que le adelanto no

desde el departamento se sigue controlando esta situación efectivamente y se seguirá controlando en el futuro una situación

que lógicamente la realizó la empresa que era la responsable

se ha controlado desde el departamento permanentemente la actuaciones que se han llevado a cabo y se siguen realizando y se seguirán haciendo controles de futuro en este ámbito y se lo decía antes pero se lo repito teniendo en cuenta el alto componente técnico de esta información le invito si tiene interés a que haga uso del derecho que le asiste a

porque desde el órgano ambiental vamos a poner todos los medios necesarios para facilitarle ese acceso yo

a los ámbitos de mi competencia y ciertamente usted me ha preguntado una pregunta clara

de miranda y la descontaminación de la zona afectada por vertidos industriales y creo que le he respondido y le estoy respondiendo de forma extensa y documentada en todos esos aspectos y de la misma forma

las actuaciones que están desarrollando desde la dirección de administración ambiental

del agua han sido adecuadas para proteger la calidad de los suelos y de las masas de agua

en su momento se produjo un vertido y por supuesto

tengo que decir también que la empresa respondió responsablemente en todo momento a las indicaciones y a los requerimientos del departamento y a día de hoy la satisfacción que tiene el departamento es que se han ido adoptando todas las medidas necesarias en su momento y sigue habiendo como le decía un control para tener la absoluta de seguridad de que no se vuelvan a dar situaciones

que sean asumibles en cuanto a la calidad de esos suelos y usted sigue con la referencia de cuándo deja de ser una zona vulnerable bueno el objetivo

preservar la calidad de las masas de agua subterránea en la medida de que hay unos límites establecidos en cuanto

de fertilizantes si se consiguen los objetivos habrá que analizarlo pero los objetivos se consiguen para mantenerlos en el tiempo no para echar por tierra el trabajo realizado en la consecución de los objetivos y que a la vuelta de la esquina tengamos otra vez que volver a declarar

porque no se utiliza adecuadamente el nivel de

eskerrik asko presidenta y le hacia la pregunta

patológico o al lehendakari con esa mezcla de optimismo y realidad que deja menos lugar

o no es un poco lo que queremos saber en el día de hoy con la vivienda no vamos bien es uno de los principales problemas de la sociedad vasca renta según el gobierno vasco de mil cincuenta euros de alquiler gipuzkoa mil doscientos sesenta euros emancipación juvenil

de alquiler por las subidas abusivas y arbitrarias en unos precios ya desorbitados y el parlamento está acompañando y hemos llegado a acuerdos

en los acuerdos para el desarrollo de la ley pero tenemos que decir hoy que estos acuerdos en muchos casos se están incumpliendo y en otros muchos se están retrasando como ese informe sobre los impactos de los pisos turísticos en el precio del alquiler o el desarrollo del índice de referencia de los precios del alquiler

del decreto de derecho subjetivo y del decreto sobre vivienda deshabitada y no sé si tiene planificado llevarlo al consejo de gobierno del palacio de miramar

una calendarización del desarrollo de la ley de vivienda y nos ha explicado que los ayuntamientos y el gobierno vasco las competencias que tiene pero ha mencionado el estatuto de gernika la ley del suelo la ley de vivienda y la ley de bases de régimen local pero bueno eso ya lo sabíamos pero no hay nada

seis meses después que tenía que estar aquí y luego este informe el informe sobre competencias y medidas fiscales seis meses después y es un informe que lo ley ayer dieciséis páginas hablan de la ley de vivienda habla del informe del observatorio de vivienda ya estaba todo eso ya estaba escrito

hay tres páginas que a letra grande y con dibujos

sobre opciones en política fiscal y además tiene el consejero de hacienda al lado que lo puede compartir con él

qué política fiscal van a alumbrar y ya le digo somos muy críticos porque aquí

entonces yo ya le digo elkarrekin podemos en las tres juntas generales respaldará políticas fiscal progresiva en materia de vivienda si sirve para movilizar vivienda deshabitada y si sirve para alquiler si sirve para armonizar alquiler público y alquiler social lo que no tengo tan claro es lo que van a hacer

y si le van a comprar el discurso de reforma fiscal también al partido y creo que con esta pregunta es lo que queríamos su valoración sobre la política de vivienda porque creemos que la situación es grave es grave en euskadi en estos momentos y que estamos bueno antes éramos

del uso social de la vivienda el uso por diez años a la caixa

de los alquileres por barrio en berlín el tripartito de izquierdas también va a limitar las subidas del alquiler son ejemplos de cosas que se pueden hacer

apostando por la vivienda pública de una manera mucho más rápida y

todos sabemos de primera mano las necesidades que existen pero no creo que lo que usted describe sea el estado real de la situación de vivienda en euskadi

de la vivienda creo que tenemos problemas problemas importantes y que la situación de la vivienda en euskadi es manifiestamente mejorable pero también le digo

nuestra posición y nuestras políticas de vivienda destacan positivamente

para mejorar en los próximos años la situación de la vivienda en euskadi pero le digo las comparaciones pueden ser odiosas pero también ilustran

en euskadi es algo menos mala no es un consuelo simplemente es una constatación y detrás de algunos datos hay un esfuerzo y también hay políticas integrales para abordar el problema de la vivienda en su globalidad por poner unos ejemplos

desde el año dos mil trece sobre el conjunto de españa y somos el cuatro coma siete por ciento de la población el índice de precios de vivienda que publica

partiendo de cien en el año dos mil quince euskadi está al ciento diecisiete coma cinco

de encabezar el ranking gran parte de las unidades familiares

el año pasado perciben ayudas de la administración sea prestación complementaria de la vivienda prestación económica de la vivienda o aes para pagar parte

esto significa que el cuarenta y seis por ciento de todos los alquileres privados cuentan con algún tipo de ayuda de apoyo público por el pago de alquiler y si además tenemos en cuenta el parque público de alquiler y el parque privado regulado

en euskadi en una vivienda en alquiler tienen o bien un alquiler social o bien ayudas públicas para pagar

el año pasado según el ministerio de fomento fuimos la segunda comunidad con más viviendas protegidas iniciadas y terminadas de madrid y en lo que se refiere a viviendas en alquiler el sesenta y seis por ciento de todas las viviendas terminadas en españa en el año dos mil dieciocho dos de cada tres fueron viviendas vascas nuestro parque público de alquiler alcanza ya las trece mil ochocientos noventa y cuatro viviendas incluido

particulares en el programa bizigune y el parque de vivienda protegida lo integran sesenta y ocho mil doscientos treinta y ocho viviendas cuarenta y seis mil noventa y dos de ellas con calificación permanente hemos puesto en marcha

y a final de año contaremos con el procedimiento administativo para abordar la declaración de vivienda deshabitada y movilizar los veinte mil ochocientos pisos estivales que se encuentran hoy vacíos conoce usted la propuesta de fiscalidad que hemos remitido a esta cámara

de la vivienda en alquiler templando los precios de los alquileres en resumen

es grave y queda mucha tarea pero reconocerá usted que algo estamos haciendo dicho esto señor martínez busque compare

propóngalo por ejemplo de cara a los presupuestos que su grupo si está tan concienciado podría proponer y comprometerse con los presupuestos

es ser capaz de diseñar unos presupuestos que tengan el foco puesto

de gobierno el contexto político lo construimos entre todos

ya que este gobierno se encuentra en minoría parlamentaria y necesitamos como decía

de algunos grupos de la oposición permítame en este sentido que le devuelva de alguna manera la pregunta a usted pero con una cierta variación señor urruzuno considera usted que el contexto político

consejeras consejeros señorías buenos días en una reciente información periodística se hablaba de un estudio ya lo conocíamos porque estaba integrado de alguna manera en el plan universitario dos mil diecinueve dos mil veintidós se firmaba determinadas cuestiones

sobre la mesa por su gravedad o por lo menos pro el riesgo para el futuro de nuestro sistema universitario

yo creo que la información era oportuna porque lo volví a poner de manifiesto

bueno que el gobierno confirme sus planes para ese futuro inmediato llega un análisis de esas

situación que se puede plantear de riesgo estamos hablando de un elemento esencial

junto con el resto del sistema educativo y de la educación la formación profesional pues estamos hablando temas esenciales

las debilidades y las amenazas están constatadas en su análisis pero el estudio al que se refería la información periodística ponía el acento vamos a recordarlo en la oferta limitada de titulaciones

porcentaje limitado de créditos en idiomas no oficiales porcentaje limitado de

de los docentes la baja proyección internacional de investigación

que veíamos es decir ahí está la situación y sí que es cierto que visto ese recordatorio de cómo estamos visto que estamos

y que en ese sentido habrá que ver por dónde tenemos que avanzar le preguntamos qué actuaciones va a llevar el gobierno vasco en la superación de esas importantes carencias

del sistema universitario vasco y de excelencia dos objetivos que se materializan a través de acciones que responden a distinta naturaleza eskerrik asko eskerrik asko

se habrá reservado para el segundo turno la contestación a la pregunta porque lógicamente lo que me ha dicho

de una cuantificación que todos conocemos pero yo le preguntaba sobre los problemas sobre las debilidades sobre las amenazas que la sociedad conoce y ha visto reflejadas los medios de comunicación a través de los propios estudios a los que hemos hecho referencia y cómo se van a abordar a este corto plazo y qué medidas va a hacer efectivamente yo también le tendría que preguntar seguramente usted me habla de

le voy a decir por qué son claramente insuficientes y además voy a entroncar con el debate que han tenido antes del presidente el señor alonso también algún otro portavoz la señora larrion con y con la consejera de desarrollo económico y le digo en el tema de la innovación es decir en el tema de la innovación está bien claro que la propia universidad

flaquea en relación con la red vasca de ciencia tecnología e innovación es decir

cuando hablábamos de esa cuestión nos referíamos a que la innovación es esencial y que estamos retrocediendo también la universidad la universidad forma parte de ese conjunto con las empresas con el desarrollo con la iniciativa política se vuelve a recordar que los fondos de investigación del gobierno vasco se cumplimentaron

o sea que es insuficiente esa cantidad esa innovación

señor barrio me sorprende que aluda al citado estudio cuando el mismo así como las carencias y los puntos fuertes

páginas cinco veintiuno y que hemos elaborado nosotros mismos

vasco se ha evaluado el plan universitario anterior la situación de la enseñanza universitaria y los distintos elementos de entorno que van a influir en su desarrollo cuyo análisis es vital para conocer en qué posición se encuentra el sistema universitario vasco

estas acciones que se plantean están alineadas con las necesidades y prioridades del país son distintas las acciones que se plantea con cada universidad y su correspondiente dotación económica

a los diferentes estados de la carrera académica del pdi desarrollo y mejora de los procesos y modelos de aprendizaje o la exploración de nuevos ámbitos

en cuanto a la tasa de abandono en el eje de formación y metodologías docentes innovadoras con elementos imprescindibles que se encuentran en su totalidad presentes en la agenda estratégica de las universidades

del dieciséis coma dos por ciento al quince por ciento titulazio bikoitzak direla eta

es decir hacemos una análisis previo detectamos las carencias y los puntos fuertes

con un incremento de un nueve coma seis por ciento de la financiación y en todo caso cabe recordar que la financiación para apoyar la mejora de nuestras universidades debe hacerse siempre

esta necesidad de impulsar actuaciones novedosas se producen en un contexto en los que son las propias universidades quien han de responder a las nuevas demandas sociales

en el cerebro de naturaleza no degenerativa ni congénita que se produce

de una fuerza externa o interna se produce por lo tanto una alteración en el cerebro que se concreta en una

pero que provoca lesiones en el cerebro quedan secuelas discapacidades de tipo físico cognitivo emocional sensorial conductual

de estas personas cuestiones que como a nadie se nos escapa tienen incidencia en el día a día de estas personas cuando estamos hablando

estamos hablando encima de procesos que afectan situaciones que afectan a niños que estos niños cuando tienen un episodio de estas características pasan por unidades de cuidados intensivos

osakidetza proporciona la rehabilitación hospitalaria ambulatoria

decía en muchos casos acaban en unidades de psiquiatría infantil estos procesos son complejos complejos procesos de rehabilitación en donde todavía persisten carencias en los

a los niños que sufren daño cerebral adquirido que son menores de dieciséis

además cada caso es distinto como también tuvimos oportunidad de conocerlo esto y estas reivindicaciones y estas demandas y esta afirmación concreta en la comparecencia también que se sustanció por la parte de la asociación

el excelente trabajo que realizan por lo tanto es muy importante

este daño cerebral adquirido infantil esta lesión en el cerebro se produce

en una persona y por lo tanto tampoco a nadie se le puede escapar que la

especial y que también es muy importante la interacción

que coordinados entre ellos actúen en esos niños en un momento

nosotros propusimos una iniciativa una proposición no de ley como decía que tuvimos que reproducir a los seis meses porque no veíamos que no se había cumplido la primera

a constituir un equipo de trabajo para elaborar un diagnóstico de la situación del caso de estos niños

en este estudio se contara con las aportaciones de las asociaciones y luego posteriormente también instábamos al departamento de salud a que en el plazo de cuatro meses elaborara un plan de trabajo de actuación dirigida a este colectivo y que tuviera en cuenta las necesidades sanitarias y sociosanitarias con el objetivo de dar esa atención

unos meses más tarde el quince de marzo de dos mil dieciséis volvemos a presentar la iniciativa y en ese caso instamos al gobierno vasco puesto que entendíamos y tuvimos información del respecto que ya había conversaciones a que se trajera el diagnóstico y el plan de actuación en el plazo

tenemos que decir que algo se ha hecho no vamos a decir

absolutamente nada pero sí que tenemos que decir que la respuesta que se ha dado por parte del gobierno a juicio de la asociación y de los colectivos afectados

de acuerdo a las reivindicaciones y a las necesidades que se pusieron en ese momento en las múltiples reuniones encima de la mesa se constituyó un grupo multidisciplinar

pero según trasladan los colectivos afectados no se tuvieron muy en cuenta las aportaciones de las asociaciones y en ese sentido señalan que no fue un documento consensuado

cuando se hace un repaso en ese diagnóstico de los recursos implicados en cada fase la fase aguda subaguda y crónica se señala

de reconocerse que hay recursos se concluye que ningún afectado ha pasado por los servicios de logopeda

y trabajador social por lo tanto creemos que las actuaciones del gobierno en esta materia

envueltas en cierta autocomplacencia en relación a los mandatos expresos

de esta cámara por otra parte

que es muy importante para trabajar todo lo que tiene que ver con la

donde el cerebro como he descrito es el principal órgano dañado en los adultos existe una clara

y programas de atención multidisciplinar y en el informe o el plan elaborado por el gobierno vasco se concluye

infantil no se garantiza esa atención multidisciplinar

que sí está de alguna forma diseñada cuando se trata de atender a adultos se señala también que en este plan no se detallan programas concretos ni planes específicos de actuaciones ni dotaciones presupuestarias por ello hemos considerado oportuno señora consejera realizar esta

y viendo que ha transcurrido ya unos años desde los debates que se produjeron en esta cámara y que siguen existiendo déficits

que necesitan o que requieren los niños que tiene daño cerebral adquirido infantil y puesto que los trabajos

si ustedes se plantean subsanar esos déficits

en relación a proporcionar como decía esa atención

que vaya sobre todo a la rehabilitación de esos niños y sobre todo que incidan en una edad temprana que es donde hay más posibilidades de recuperación besterik gabe eskerrik asko

eguerdi on guztioi los niños y niñas con daño cerebral adquirido sufren las consecuencias de una lesión cerebral como ha mencionado la señora garrido

señora garrido como usted muy bien ha señalado estos niños y niñas afectados por daño

presentar déficit físicos de tipo motor o sensorial o secuelas que les afecten a la expresión oral o a la comprensión en otras ocasiones o simultáneamente presentan alteraciones de la conducta o emocionales como consecuencia pueden presentar una disminución de la autonomía para realizar las actividades que serían habituales para su edad en los casos más graves incluso puede afectar a las tareas cotidianas o a los autocuidados lo que conlleva cuidados especiales pero incluso

estas secuelas no son tan fáciles de detectar ni de evaluar ni de cuantificar aunque son percibidas por las personas con las que conviven entendemos las graves consecuencias que el daño cerebral adquirido produce en el entorno familiar también en el ámbito social y educativo también entendemos el esfuerzo y la responsabilidad que supone tratar

en cualquiera de estos ámbitos y lo difícil que puede resultar asumir que una situación así puede ser permanente y en muchos casos irreversible

le puedo asegurar nos esforzamos por ofrecerles una atención integral lo más completa y adaptada a sus necesidades sanitarias mejorable como todo proceso asistencial pero contando con múltiples profesionales y de calidad y donde la neurología infantil y la rehabilitación son la base todo es mejorable pero le puedo asegurar

es motivo de reflexión continua porque nuestro objetivo cada día es mejorar y seguir hacia adelante entendemos que su interpelación comparte este fin este objeto de mejora continua de osakidetza la compartimos todos ustedes

el conjunto de profesionales las familias todos nos esforzamos en mejorar que los niños y niñas que padecen daño cerebral adquirido tengan

a detallar aspectos de la atención que ofrecemos a estos niños y niñas y también a las personas con las que conviven el veinticuatro de mayo del año dos mil dieciséis como ha mencionado el departamento de salud remitió a esta cámara el plan de actuación para una atención integral

necesidad de un abordaje multidisciplinar como el nombre indica apostaba por una atención

asistencial pero también en colaboración con el ámbito social y educativo

y educativo porque no debemos olvidar que este daño

no es una enfermedad sino una consecuencia sus repercusiones en las necesidades del niño y en su incorporación a las actividades cotidianas es lo que debemos mejorar y afortunadamente para paliar esta situación en euskadi contamos con una gran experiencia en colaboración

educativa hay que señalar que este plan fue elaborado por un grupo de trabajo para abordar y analizar la situación en ese momento detectar áreas de mejora

líneas comunes de acción en el contexto de elaboración de este documento se mantuvieron reuniones con las asociaciones de afectados y las familias de estos niños y para niñas para recoger sus sugerencias esta

el plan de actuación elaborado es en el que nos hemos guiado hasta ahora y en el que queremos seguir sus pasos

de actuación estableció la necesidad de interactuar de forma coordinada

social y educativo y hoy en día seguimos considerando

esta coordinación como un aspecto clave para garantizar una atención integral a cada menor con este tipo de necesidades especiales he de insistir en que este modelo de intervención con los tres sistemas implicados sanitario social y educativo es el modelo de atención al conjunto de niños y niñas que tienen necesidades especiales en nuestra comunidad es consistente y a la vez admirado y seguido por otras comunidades nuestro modelo trabaja cómo poder dar respuesta a las necesidades de cada caso

y a la coordinación de los servicios clínicos implicados en

la enfermedad de base de estos procesos trabajamos en reducir las patologías causas de este daño cerebral el objetivo de la red asistencial está en prevenir las secuelas en rehabilitar la anoxia cerebral un mejor tratamiento de los tumores cerebrales

la prevención y tratamiento del accidente cerebrovascular y la atención a los traumatismos craneoencefálicos entre otros

y que dejan como secuela el daño cerebral adquirido actualmente

están implicados múltiples servicios principalmente neurología pediátrica y rehabilitación infantil de hecho en este momento

por psicología clínica que podría beneficiar a nuestros menores y a sus seres más próximos en aquellas situaciones de enfermedades graves

y una red de salud mental con profesionales y conocimiento para llevarlo a cabo otra línea de trabajo con menos visibilidad pero no de menor importancia es identificar los casos en historia clínica en que compartimos todo el sistema sanitario esto es una recomendación del grupo de trabajo del año dos mil dieciséis y a partir del cual se añade la impresión diagnóstico y nos permite de esta forma asignar

para codificar de forma específica esto nos permite exportar los datos a través de los sistemas de análisis de información corporativas utilidad para los pacientes también para los gestores y para el conjunto de los profesionales porque nos permite hacer un seguimiento de los casos

sus necesidades y eso son mejoras sustanciales y objetivas que se han obtenido gracias a este plan del año dos mil dieciséis por otra parte

la sociedad española de neuropediatría ha mantenido reuniones de consenso para tratar el tema

en concreto de los hospitales universitarios de donostia y de cruces de hecho estas osi

han desarrollado protocolos internos específicos para la activación de este código ya que el grupo de consenso de la propia sociedad española de neuropediatría acordó qué es cada centro cada organización sanitaria la que debe

su código para responder de forma más adecuada a las necesidades específicas de cada zona geográfica y

he mencionado y quiero resaltar la importancia de la coordinación interinstitucional tanto del ámbito sanitario como del social y del educativo

estas actuaciones en este sentido destacar las líneas estratégicas de atención

unas líneas que incluyen a estos niños y niñas con necesidades especiales como colectivos diana identificados para el desarrollo de este tipo de atención y así está definido en el decreto trece barra dos mil dieciséis he mostrado algunos pasos que hemos dado hacia delante mejoras pero sobretodo el interés del departamento

una atención integral y coordinada a los niños y niñas que padecen en euskadi este daño cerebral adquirido seguimos trabajando conscientes de que hay

pero también que debemos reconocer dónde estamos afianzarlo y avanzar eta lanean jarraitzeko deitzen gaituzten guztiekin

gracias señora consejera por las explicaciones este grupo cuando trajo estas iniciativas para debate en esta cámara allá por el año dos mil quince y también se sustancia aquí la comparecencia

por estos niños y que también todos sabemos que

cambiar sus vidas y cómo nos trasladaban que en un primer momento la atención a los niños que tienen un o son diagnosticados como un daño cerebral adquirido

pero luego cuando estas familias se iban con sus niños a casa pues no tenían una atención cubierta y sobre todo

que se producían en el cerebro pues había cuestiones

rehabilitación que tenían que ser financiadas por su cuenta y que no eran sufragadas por el sistema público de salud por eso consideramos conveniente traer como digo dos iniciativas hubo que presentar dos iniciativas y el mandato era muy claro un estudio diagnóstico pero aquí sí que nos trasladas señora consejera o nos trasladaron ya en su momento porque obviamente esto ya

sobre la mesa que no se tuvieron en cuenta las aportaciones específicas que hicieron los colectivos y en ese sentido ellos no están de acuerdo con ese estudio diagnóstico que se realizó en su momento y en cuanto al plan de actuación para la atención integral

está claro que estamos ante casos complejos que además cada caso es distinto como además nos lo dejó muy claro la propia asociación con graves consecuencias

y una colaboración entre el ámbito social y educativo sobre todo

concretos así como una actuación coordinada también entre

sanitario y educativo pero las familias nos siguen trasladando que a día de hoy siguen estando unas cuestiones

de rehabilitación y de apoyo que necesitan esos niños que no están cubiertos y no se dan los recursos correspondientes a la logopedia a la psicología y a todo el tema ocupacional por lo tanto creemos que ahí sigue

hemos considerado volver a traer este tema a esta cámara reconocemos los avances pero todavía consideramos que esos avances son insuficientes para proporcionar la atención integral que precisan estos niños una atención integral

distintos profesionales y distintos ámbitos ellos nos decían que tampoco había programas

vemos que este es otro de los déficits por eso creo que es

para darle un impulso ya definitivo a las deficiencias

presenta la atención a estos niños en nuestra comunidad autónoma en el país vasco yo creo que es un momento para la reflexión y que ustedes parece que empezaron a hacer algo pues que continúen haciendo

que las familias afectadas y que los niños necesitan en nuestra comunidad autónoma besterik gabe eskerrik asko eskerrik asko garrido andrea erantzuteko murga andrea zurea da hitza

con las familias de los niños y niñas que padecen daño cerebral adquirido

reuniones y otros espacios de comunicación desde el año dos mil quince y continúa nuestra voluntad de seguir contando con una vía permanente de contacto

recogido frutos de este trabajo conjunto me gustaría volver a remarcar que nosotros ponemos especial énfasis en la coordinación

interinstitucional de los ámbitos sanitarios social y educativo que deben complementarse no todo depende del sistema sanitario

el mecanismo de coordinación de la atención está regulado a través del decreto trece barra dos mil dieciséis de intervención integral en atención temprana en euskadi en este sentido me gustaría destacar que en él se establece como marco de actuación

educativo en el cual a través de los equipos de valoración en atención temprana

de estos ámbitos y que es individualizado y ajustado a cada caso y a partir de ahí se derivan derivaciones y planes de intervención concretos

conjuntos establecidos para las necesidades sanitarias sociales y educativas de forma simultánea coordinada y estable y ajustada a un criterio de continuidad

de esta manera los casos de daño cerebral adquirido infantil

serán tributarios de esta evaluación e intervención conjunta que llevan los evat por

solicitadas estas valoraciones además de estos dispositivos quisiera resaltar que existe también a nivel institucional entre los departamentos del gobierno vasco una comisión mixta y salud a la que llegan aquellas situaciones para compartir y gestionar de forma conjunta y de forma específica aspectos del daño cerebral adquirido infantil

llegaría a individualizarse en esta comisión y se tendrían en cuenta las valoraciones también

niños y niñas para finalizar me gustaría remarcar que a corto plazo está previsto que se reúna de nuevo este equipo de trabajo creado en osakidetza para continuar facilitando los canales de comunicación y coordinación

y familiares que en definitiva ayudan a ofertar una atención integral e integrada y conocer sus necesidades en nuestra opinión

ha implantado desde el inicio de este grupo este es el marco en el que continuar avanzando en el intercambio de experiencias documentación necesidades posibilidades de actuación etcétera y poder así contribuir con los diferentes equipos profesionales

claramente implicados en decidir actuaciones y formas que lleguen a los pacientes específicos y coordinados de atención sanitaria pero también social y educativa tal y como creemos que debe ser el modelo

consejera compañeros y compañeras parlamentarios

echando un vistazo investigando el tema de la única osi la única ordenación sanitaria integral

cuya clínica de la asunción se ocupa de la hospitalización y la atención especializada y los centros de salud de tolosaldea le derivan los pacientes que así lo necesiten

antes de las campañas electorales para tener mayor argumentación para intentar discutir estos temas próximamente y no encontré nada

no encontré beneficios no encontré toda la ubicación financiera

como se hizo con la vinculación con el onkologiko que es plantear una auditoria el departamento de salud se habrá planteado hacer una auditoria

y así lo pregunto el departamento de salud ha hecho o se ha planteado

el departamento de salud no es competente para realizar ningún tipo de auditoría financiera ni a organizaciones públicas ni por supuesto a entidades privadas

el departamento de salud por supuesto que ejerce un control sobre la clínica de la asunción en este caso a través de la delegación territorial de gipuzkoa

para la prestación de servicio de atención especializada para pacientes de la osi tolosaldea

dentro del apartado nueve de este concierto referente a la evaluación de calidad y monitorización y en concreto en el punto nueve punto tres

se realizará anualmente con el ejercicio finalizado una evaluación económica del centro en base a los siguientes informes aportados por la empresa

entre otros aspectos su evolución económica causa de las variaciones existentes entre ejercicios así como cuantos aspectos se consideren necesarios resaltar

en ese mismo punto nueve punto tres se añade que se entregará en la delegación territorial antes de que finalice

y en él habrá un informe de auditoría profesional independiente por una empresa externa que señale la situación económica del centro señor uria las cuentas anuales son preceptivas para todas las empresas y tanto ellas como el informe de auditoría deben ser depositados

y por tanto a disposición de quien lo estime conveniente eskerrik asko eskerrik asko murga andrea jarraian uria jaunak

conocemos el contrato programa en el que entra la clínica de la asunción como es correspondiente en todas las osi de osakidetza pero no

en el registro mercantil hay que comprarlas ni en el departamento

ningún dato económico muy brevemente son tres cuestiones que nos preocupa si no jamás

más de diez años de conflictos como es conocido la colaboración público privada en las políticas sociales tienen problemas de transparencia tienen problemas de precariedad laboral

la existencia de auditoría alguna ni privada ni pública no nos consta la situación financiera de la clínica ni de sus deudas ni de sus beneficios

y su empresa propietaria inviza ha abierto cuatro centros el centro médico bidasoa en irun el centro médico de ordizia en ordizia

en tolosa en estos centros usted va a la página web y dice que

todo el arco de seguros privados así como la profundización y extensión del trabajo con una amplia red de mutuas laborales y seguros privados además de pertenecer a unespa

y pone toda la parrilla de especialistas de la clínica de la asunción a disposición

las instalaciones que paga osakidetza mediante convenio los sueldos de los especialistas que paga en parte osakidetza el departamento de salud mediante convenio el equipamiento que paga osakidetza mediante convenio

para estas cosas para la atención público privada pero más privada que pública por si acaso la segunda cuestión es que son una ingeniería de empresas cuatro empresas asociación médica tolosa

entre otras que tienen una ingeniería financiera para tesis doctoral donde se reparten beneficios y pérdidas

con hacienda con la seguridad social y con fogasa que ya quebró en el noventa y cuatro y yo digo si nuestra consejera quiere hacer pública la clínica de la asunción
que haga una auditoría antes no vaya a encontrarse un muerto eskerrik asko uria jauna eskerrik asko amaitu zaizu denbora jarraian erantzuteko

señor uria complementariamente a mi respuesta anterior le diré que en la delegación territorial de gipuzkoa se revisan mensualmente con detalle las facturas emitidas por la clínica

como a la actividad realizada también en lo que ha señalado de mutuas el trabajo que desempeña la clínica de la asunción con mutuas laborales seguros

hospital de osakidetza es decir como centro referente que es trabaja con estas entidades al igual que hacen el resto

además el contrato programa que también ha mencionado determina los servicios clave y las condiciones de calidad que también son similares

se evalúan los resultados conjuntos con la clínica de la asunción de hecho los resultados de calidad del año dos mil dieciocho de la osi tolosaldea

la delegación territorial de gipuzkoa ha recibido las cuentas correspondientes

eguerdi on denoi eskerrik asko mahaiburu andrea señora san josé los trabajadores vascos ganan de media un veinticuatro por ciento más al mes que las trabajadoras como ganancia media anual un hombre vasco gana treinta y uno mil euros frente a los casi

de una mujer lo que supone siete mil quinientos euros menos

esto lo reafirma el reciente informe elaborado a iniciativa de su propio gobierno sin embargo lo que no detalla el informe elaborado por la profesora de la rica es cuál

en la subcontratación de las administraciones públicas vascas ya sean ayuntamientos diputaciones o en los contratos públicos que dependen del propio gobierno vasco casualidad o no tampoco los informes previos y el marco de la estrategia y el plan operativo

refleja nada al respecto sabemos que la brecha salarial se debe en la mayoría de las ocasiones

trabajan en sectores peor pagados y menos horas por ser las que más contratos parciales tienen de hecho una de cada cuatro mujeres trabajadoras vascas el veinticinco por ciento tiene un empleo a jornada parcial un porcentaje que cae hasta el siete por ciento en el caso de los hombres es decir

y no siempre voluntaria y esto afecta de forma directa a las diferencias salariales las mujeres ocupan categorías laborales menos valoradas económicamente

dado que las mujeres tienen mayores índices de parcialidad y de temporalidad en sus contratos de trabajo

llevamos desde el inicio de esta legislatura presentando propuestas concretas para encaminarnos a erradicar la brecha salarial medidas que cuentan con el respaldo tanto de los sindicatos

como de los agentes sociales sin embargo no hay en la estrategia que presentó el gobierno ni una sola acción clara por resolver el problema de la brecha salarial en su casa y en el ámbito de responsabilidad

públicas vascas en ámbitos que son de su entera competencia cuanto menos es sintomático de que son ustedes muy dados a sacar planes y estrategias pero tienen también una asombrosa facilidad para no aplicarlos y para no

es que no les pedimos una intervención que suponga empeorar la situación de las mujeres trabajadoras vulnerando sus derechos fundamentales como está sucediendo ahora mismo sino una intervención

que de unas perspectivas feministas y de respeto de todos los sindicatos y las trabajadoras de las que tanto

predicar con el ejemplo como bien sabe usted señora san josé hay muchos conflictos laborales en euskadi que tienen que ver con la subcontratación de las administraciones y con trabajos feminizados además de algunos centrados

y no vemos que su departamento participe en tratar de poner soluciones a los mismos por ejemplo

el convenio sectorial de ayuda a domicilio de bizkaia donde tienen

de los servicios como los ayuntamientos titulares del mismo están enrocados en el inmovilismo y son solo dos de los ejemplos que usted tiene con respecto a la brecha salarial pero usted sabe que hay una larga lista tenemos también

y los centros de día en gipuzkoa que por el momento han realizado setenta

entre dos mil dieciocho y dos mil diecinueve y a pesar de la oposición de las distintas administraciones públicas se consiguen acuerdos en el ámbito de la administración pero hay que reconocer que no lo hacen porque haya una posición proactiva de su gobierno

todo lo contrario se avanza en la reducción de la brecha salarial no porque ustedes se muestren a favor de solucionar este tipo de conflictos sino por la voluntad de las trabajadoras

que las apoyan en todos estos conflictos nos preguntamos qué tipo de intervención ha tenido su departamento para resolverlos qué papel se ha ejercido de mediación o de algo parecido y en el caso de los servicios subcontratados por las administraciones si ustedes han hecho algo o van a hacer algo para que existan condiciones de trabajo decentes por el contrario lo que estamos viendo y lo que vemos en los últimos meses

claramente abusivos y una ampliación de estos servicios mínimos por motivo del alargamiento de las huelgas como forma de debilitarlas como es el caso de las residencias de gipuzkoa cuando lo hicieron previamente

y otras muchas e incluso la determinación de servicios mínimos extraordinarios de limpieza general

la limpieza de comisarías y juzgados de gipuzkoa o el caso del ayuntamiento de elorrio pero también

empezando por la huelga del ocho de marzo del dos mil dieciocho donde el tribunal superior de justicia del país vasco les obligó a reducir los mismos porque afectaban al ejercicio del derecho fundamental de huelga concretamente a las trabajadoras gerocultoras

muy gráfico el comportamiento de su departamento

ante una política generalizada de su departamento y de este gobierno de dictar servicios mínimos abusivos en servicios que solo son esenciales cuando las mujeres luchan contra la precariedad y para acabar con la brecha salarial nosotras nos preguntamos por qué

explicación que encontramos es que su objetivo es limitar el derecho de huelga de las mujeres

así de claro y a la hora de fijar los servicios mínimos les conceden ustedes una relevancia a los trabajos de cuidado y limpieza dejando claro que son labores imprescindibles e irrenunciables

que no se pueden dejar para el día siguiente sin embargo si tan importantes son estos trabajos por qué no los ponen en valor tal y como lo merecen por qué no toman ustedes medidas

si estos servicios son esenciales para la comunidad por qué las mujeres que trabajan en ellos lo hacen en la precariedad no es casualidad que los servicios mínimos más altos se establezcan en los sectores más feminizados y más precarizados todo ello por no hablar de la situación estrambótica de establecer

como los ratios de prestación que se establecen en los pliegos de condiciones

y por ello podemos limitar el ejercicio de la huelga pero sin embargo en la licitación de los servicios

de las mujeres al máximo su gobierno y su departamento solo se acuerdan de la calidad de estos servicios cuando las mujeres que los ofrecen van a la huelga para mejorar sus condiciones de trabajo

dice que quiere eliminar en definitiva señora san josé el gobierno vasco y su departamento por un lado

o muestra su aparente preocupación ante este problema social pero por otro lado son los mismos responsables institucionales que con su política de subcontratación de servicios públicos con su política de posicionarse contra las huelgas que se realizan para enfrentarse a estas injusticias perpetúa

con usted como consejera de trabajo y justicia y entendemos que tiene usted una responsabilidad máxima en esta cuestión estas mujeres

que no llegan ni a un salario mínimo decente no se merecen el trato que reciben por parte de su gobierno y de su departamento nosotras rechazamos rotundamente las actuaciones de las diferentes administraciones y gobiernos locales forales y autonómicos dirigidas a cercenar y vulnerar el ejercicio de derecho de huelga de estas trabajadoras como también rechazamos que se puedan dictar órdenes de servicios mínimos

a quien se opone a las políticas de subcontratación y sus efectos de la brecha salarial a quien se opone ante algo injusto puede parecer a la vista de todo esto que el gobierno vasco y su departamento de trabajo y justicia se están empleando a fondo

la explotación de mujeres y apoyar a las empresas subcontratadas por las administraciones públicas vascas y digo

solo por el ejercicio de darle a usted la oportunidad de demostrar con hechos no con palabras que esto no es así así que usted dirá

eskerrik asko presidente andrea jaun andreok eguerdi on señora garcía me interpela sobre las medidas concretas que vamos a tomar en el departamento de trabajo y justicia para intervenir en los conflictos y huelga en sectores feminizados para que

que pueden estar relacionadas pero que no tienen la misma respuesta

sectores feminizados que están en huelga o en otro tipo de conflicto y mi respuesta no puede ser más clara nuestra intervención se sujetará a las competencias que nos asignan las normativas vigentes somos conocedores de los conflictos a los que usted se refiere

participación que no es otra que la mediación supeditada a que las partes en conflicto o las partes negociadoras de un convenio lo soliciten formalmente y con acuerdo de las mismas la legalidad así lo establece y por nuestra parte no hay otra posibilidad de intervención

y la del departamento de trabajo y justicia favorable a impulsar la negociación colectiva a todos los niveles sectoriales territoriales y de empresa

y estimular la negociación colectiva como herramienta básica para conseguir un desarrollo económico

pero en ningún caso la administración debe interferir en la plena autonomía de los sindicatos y organizaciones empresariales para establecer mediante acuerdo las condiciones de trabajo es el marco bipartito de la negociación colectiva entre representantes de trabajadores y trabajadoras y de las organizaciones sindicales en el que se dan los avances y soluciones

y también es el ámbito en el que deben resolverse los conflictos por cierto este miércoles pasado nos encontramos con una buena noticia como es el acuerdo alcanzado entre las personas que desarrollan labores de limpieza en los palacios de justicia

se ha hecho lo correcto desatascar un conflicto que duraba ya nueve meses y dar una salida a las demandas laborales de las personas empleadas mediante negociación entre las partes

para que la brecha salarial no siga aumentando en euskadi a esta cuestión le voy a responder taxativamente el conjunto del gobierno vasco no solo el departamento de justicia trabaja para eliminar la brecha salarial existente en euskadi

con procurar que no aumente voy a detallarle las acciones que hemos emprendido en el departamento de trabajo y justicia con el objetivo de eliminar la brecha salarial

ya he dado debida cuenta en este parlamento y en otros foros al inicio de esta legislatura nos propusimos como un objetivo prioritario la lucha contra el fraude en la contratación

debería dirigirse a la consecución de este objetivo la temporalidad sigue siendo alta en nuestro país usted lo ha dicho y lo mismo podemos decir de la contratación a tiempo parcial referida a la que se da involuntariamente al inicio de la legislatura indique que la lucha contra el fraude en la contratación era una lucha por la igualdad

porque la temporalidad y la contratación a tiempo parcial afecta más a mujeres que a hombres son más de doce mil los contratos que hemos logrado transformar

cuando digo transformar significa que han debido

y en relación a la contratación parcial cerca de un quince por ciento del total

estas son acciones que insisto fueron adoptadas en el trabajo planificado de la inspección y seguimos con ellas aunque hoy estén incluidas en el plan del gobierno contra la brecha salarial en este sentido me habrá escuchado también comunicar en el parlamento la creación de unidades especializadas en igualdad en los tres territorios históricos de euskadi por parte de la inspección de trabajo estos son pasos firmes dirigidos a la reducción de la brecha salarial que darán sin duda frutos en el tiempo

trabajando en relación a las personas empleadas de hogar sector que ha sido objeto de frecuente atención en este parlamento sin ir más lejos el pasado pleno de control

a petición de la señora etxebarrieta de los trabajos que hemos realizado respecto a ese sector del trabajo de personas empleadas del hogar las camareras de piso también fueron incluidas entre las acciones planificadas de la inspección de trabajo el año dos mil dieciocho se realizaron múltiples

que algo tuvieron que ver en la resolución de conflictos y movilizaciones de varios establecimientos pero como usted bien sabe la lucha contra la brecha salarial también debe ocupar otros aspectos

para que se desarrolle una prevención de la salud y seguridad con perspectiva de género que es un hecho en todos y cada uno de los capítulos y temáticas que elabora osalan

y desigualdad de la mujer en el mercado de trabajo existe en todo el mundo con mayor o menor intensidad también advierto que no es solo una preocupación del gobierno ustedes lo expresaron claramente al aprobar por unanimidad una iniciativa de impulso al gobierno

de tal forma que el consejo de gobierno aprobó el pasado mes de noviembre la estrategia y plan de acción contra la brecha salarial que tiene como objetivo afrontar las múltiples causas que dan lugar a la brecha salarial a través de una batería de acciones a corto y largo plazo voy a citarle las actuaciones de mi departamento en el plan operativo

la brecha salarial y que estamos desarrollando plan específico de la inspección de trabajo de igualdad retributiva programa de formación específico para el personal de inspección buzón virtual para informar sobre posibles discriminaciones salariales sensibilización e información sobre el derecho

plan específico de inspección de trabajo de igualdad inclusión de medidas de conciliación corresponsable de la vida personal

en la mesa de diálogo social racionalización del horario en el sistema productivo vasco mesa de diálogo social elaboración de un estudio que delimite el concepto de trabajo de igual valor para garantizar el principio de igualdad retributiva

en la estrategia vasca de seguridad y salud en el trabajo creación de un registro vasco de planes de igualdad fomento de la formación en materia de igualdad entre agentes del ámbito social mayor sistematización y transparencia en los procesos de selección promoción y de valoración de puestos en las empresas

mayor transparencia salarial y mayor igualdad en las empresas

establecimiento de cláusulas sociales para la priorización de las empresas que fomenten la conciliación de la vida personal familiar y laboral efectivamente este es un plan ambicioso que seguimos desarrollando con el objetivo que usted nos plantea en la interpelación

como le he dicho antes y no solo no aumentando la brecha salarial en euskadi como usted señala en su interpelación eskerrik asko

usted me habla del plan operativo de brecha salarial de las iniciativas que se plantean desde su departamento en el plan de

con campañas específicas que incluyen muchos temas importantes planes de igualdad discriminación

o acceso al empleo de los cuales la auditoria salarial es solo uno de ellos de verdad esto no da ni para una persona inspectora más luego proponen dedicar setenta y cinco mil euros al año para la conversión de contratación temporal

y eso es uno coma cinco personas inspectoras más y más le recuerdo que nosotras en los anteriores presupuestos ya pedíamos una partida para aumentar en cuarenta

la rechazaron luego nos hablan de un plan de choque de ciento cincuenta mil que con estas cantidades parece más un plan de amortiguación dedicarán

a la inspección de trabajo y otros cincuenta mil como plan de choque le parece de verdad esta cantidad suficiente

de un nuevo estudio le dedican ustedes más dinero a una campaña informativa en los medios de comunicación ochenta mil euros a año que los setenta mil euros del plan de choque el buzón de fraude laboral

es inútil mucho más si hablamos de la subcontratación de servicios por las administraciones públicas estas cantidades son claramente insuficientes hay acciones que no están dotadas financieramente y que la inclusión de las cláusulas sociales en la contratación pública del departamento y en general de los poderes adjudicatarios de seguridad y salud laboral en clave de género mejorar

en el acceso al empleo para incrementar los recursos humanos necesarios para hacer a este fraude usted me hablaba también de que no se reunían

pueden convocar reuniones para promover soluciones de acuerdo sobre todo cuando son las propias administraciones

están gestionadas por sus socios de gobierno para hablar y son responsables ustedes de esas condiciones de trabajo sí pueden convocar reuniones no entiendo porque

claro claro que nos alegramos pero de verdad cree que ha sido gracias a la labor de su departamento

de las trabajadoras y de los sindicatos ustedes lo que han hecho con los servicios mínimos ha sido vulnerar y cercenar

no se reúne con los sindicatos para el establecimiento de servicios mínimos cuando estos son constantemente discutidos por los propios sindicatos en ningún caso han dado audiencia con los servicios mínimos extraordinarios a o las ampliaciones de los mismos en las últimas

no respetan una mínima proporcionalidad en la fijación de estos servicios mínimos

limitan la huelga en servicios que solo son esenciales cuando las mujeres luchan contra la precariedad y para acabar con la brecha salarial aunque lo peor es que no respetan los criterios que otros gobiernos anteriores respetaban

con los sindicatos representativos sobre regulación de servicios mínimos criterios de participación sindical en la determinación y regulación de los servicios mínimos de resolución de las discrepancias

ustedes imponen los servicios mínimos poniendo toda la carga en limitar el derecho de huelga en vez de realizar un trabajo de mediación de influir para resolver los conflictos y dignificar las condiciones de trabajo de las trabajadoras realizan mucha propaganda mucha acción y desarrollan una serie de medidas y de acciones que están dirigidas a evitar los efectos de las huelgas es decir si estamos en la misma línea

y que hay que reconocer que estos conflictos ponen sobre la mesa lo que no podemos hacer es presionar dentro de estos conflictos y hacer incluso vulnerar los derechos de las trabajadoras con

sí que las hay reunirse esta en su mano y la cuestión de los servicios mínimos a la que no

entonces si tenemos y quiero creer que usted

pero es que usted tiene los medios y tiene la responsabilidad y luego en la realidad no hace nada y cuando surgen conflictos en vez de solucionarlos

nos permite la legalidad vigente ninguna institución

nuestra única intervención puede desprenderse de la solicitud conjunta de las partes ya se lo he dicho de no darse esa propuesta

nuestra labor de mediación en situaciones de conflicto se reduce a establecer los servicios mínimos correspondientes en el caso de que se convoque huelga

equilibrar ese derecho a la huelga con el resto de derechos de carácter fundamental de la ciudadanía y tienen que estar regidos también por esos principios de proporcionalidad

los servicios mínimos no tienen por objetivo resolver huelgas de hecho no lo hacen en ningún caso por otra parte cuando alguna de las partes considera que se han adoptado medidas extraordinarias que vulneran alguno de los derechos que les asisten usted lo ha dicho

pues es en estos procesos judicializados donde los jueces

quiero también insistir señora garcía en la importancia que tienen las acciones encaminadas a luchar contra la brecha salarial así como la negociación colectiva

bipartito la lucha contra la brecha salarial es un asunto en el que debe implicarse toda la sociedad y que en el terreno institucional requiere una intervención tripartita

masculinizados a las mujeres fomentar la conciliación corresponsable haciendo que los cuidados de niñas y mayores sean repartidos por igual entre hombres y mujeres impulsar las medidas de igualdad en las empresas a través de la

medidas o temas que requieren la conjunción de medidas promovidas por el gobierno con el acuerdo y respaldo de todos los agentes sociales por eso además de impulsar esa estrategia y plan de acción contra la brecha salarial se ha creado en el seno de la mesa de dialogo social un grupo de trabajo específico de igualdad de género

entre otras cosas se dedica a hacer seguimiento y evaluación del desarrollo del plan de acción

garcía es preciso construir sociedades más igualitarias conseguir la concienciación del conjunto de la ciudadanía contar con organizaciones sindicales que den prioridad a esta lucha en el marco de la negociación colectiva y con empresas que tengan clara su responsabilidad social

señora garcía que los servicios mínimos sean más elevados en los sectores feminizados en ningún caso

los derechos fundamentales y tratar un equilibrio las mujeres no están explotadas por el departamento señora garcía me dice usted que las mujeres están explotadas en situaciones abusivas en limitar el derecho de huelga de las mujeres desde luego es intención de este departamento hacer una cosa semejante espero que desde luego con esta intervención le haya dado cuenta de nuestras acciones y haberle convencido de nuestras limitaciones

a este pleno de control que me había formulado con idéntica justificación por el procedimiento de pregunta para su respuesta escrita que tiene un plazo de respuestas hasta el diez de julio y de la cual tendrá contestación a todas las cuestiones que plantea en aquella me hacía seis preguntas en esta como dicta el reglamento de la cámara

de una intuición como es la diputación foral de gipuzkoa y en concreto sobre su no asistencia a una reunión en la que comparecieron empresarios representantes sindicales

colectivo como es el generado en el ámbito de las residencias para personas mayores en gipuzkoa en primer lugar le diré que no considero oportuno pronunciarme sobre la posición que adoptó la diputación foral de gipuzkoa

que quien debe dar cuenta de su actitud es la propia institución interpelada

diputación foral de gipuzkoa pero sí puedo relatarle nuestra

de personas mayores en gipuzkoa tampoco voy a pronunciarme sobre si la diputación foral de gipuzkoa es parte o no involucrada en el conflicto

a la legislación vigente que dicta que para la firma de un convenio colectivo se requiere el concurso de las organizaciones sindicales y empresariales con representatividad en el sector

más concretamente en los artículos ochenta y siete y ochenta y ocho en primer lugar quiero recordarle que la función de intermediación que compete al departamento de trabajo es intervenir en los procesos de negociación siempre y cuando lo admitan

la intermediación solo es posible si lo piden las dos partes y están de acuerdo en ello es decir representantes de las y los trabajadores y las organizaciones empresariales

estaremos abiertos a cumplir con nuestra responsabilidad pero dentro de los límites que nuestras competencias imponen

trabajo una reunión sobre la situación del sector de residencias de tercera edad de gipuzkoa y esta convocatoria se produjo por dos razones la primera porque el sindicado ela nos la había solicitado y la segunda porque el propio

entre los días diecisiete de junio y doce de julio y al tratarse de un sector considerado como esencial a efectos de la huelga estimamos importante sondear

zuk hemen esan diguzu que no le corresponde a usted pronunciarse si pronunciarse nos ha dicho varias cosas a la vez porque usted convocó esa reunión

es porque entendía que era necesario convocarla y usted convocó a las partes implicadas en ese conflicto

a la diputación a la patronal y a los sindicatos a los tres

no lo sé pero la reunión estaba convocada para desbloquear la situación de la negociación colectiva de las residencias

orduan bai hartu zenuten parte eta orduan bai foru aldundiak egindako eskariari erantzun zenioten y yo no sé si en aquel momento a usted no le pareció preocupante dentro de esos datos cuál era la situación que tenían esas mujeres cuáles son las condiciones laborales en las que desempeñan su trabajo estas mujeres que ahora están en huelga porque

han estado ausentes en todo esto san josé andrea

que ya va siendo hora de resolver no sé si el lehendakari cuando vaya ese global forum de política high level política esa va a explicar allí cuál es

paralelamente a la convocatoria que hicimos desde la dirección de trabajo con el objetivo que ya le he descrito existe

reunía a las centrales sindicales y organizaciones empresariales en la sede del consejo de relaciones laborales de donostia por nuestra parte consideramos que no debemos convocar más reuniones

para llegar a acuerdos entre los agentes sociales por cierto una mesa que ha abandonado el sindicato ela

de las actas de reuniones de esa mesa la discrepancia estriba en la diferente prioridad que dan los sindicatos

unos sindicatos consideran que es prioritario el sectorial y que no existe para las residencias de mayores mientras que ela pretende simultanear el sectorial con los de empresa
no voy a entrar a valorar estas posiciones pero es conocida nuestra apuesta preferente por los convenios sectoriales eskerrik asko eskerrik asko san josé

entre otras peticiones la oea pidió que se repitieran las elecciones en estos diez años lejos de recuperar la normalidad

hoy una mayoría social demanda la salida de juan orlando hernández del gobierno nuevas elecciones democráticas y que pare la represión que ejercen el ejército y la policía contra la población civil

y que aunque estaban compuestas por diferentes personas centroamericanas

mientras tanto las personas que quedan en el país intentando construir una vida digna en el territorio y protestan por unos servicios públicos de calidad como son la educación y la sanidad

en estos tres últimos días de protesta ha habido al menos tres muertos más de una veintena de heridos graves y numerosos detenidos